eskatzen dizuet y entrando en el punto entrando en materia voy a empezar esta proposición no de ley sobre la subida del salario mínimo contando una historia como suelo hacer habitualmente imagínense que vivimos a orillas de un río

que mueve el molino de la aldea y de repente hay una sequía se pasa mucho tiempo sin llover y poco a poco el río lógicamente se va secando

lógicamente las expectativas nos llevan a pensar que cuando vuelva a llover el río volverá a bajar cargado de agua volveremos a beber y volveremos a usar el molino

sigue seco como mucho un hilillo de agua qué es lo que está pasando seguimos confiando en que las lluvias vuelvan a renovar el caudal del río pero sigue lloviendo y el río sigue seco vamos a investigar qué es lo que pasa aguas arriba y nos damos cuenta de que en el tiempo de sequía ha hecho una toma clandestina una toma ilegal aguas arriba del río y está desviando el cauce y por tanto por mucho que llueva

a nuestro pueblo eso es un poquitín lo que ha pasado con la crisis económica efectivamente hubo un problema de decrecimiento efectivamente hubo un colapso económico en casi todas las sociedades del planeta y la expectativa era que cuando el crecimiento volviera que cuando el pib volviera a crecer

bajarían caudalosas y se volvería a repartir más o menos generosamente el agua porque tampoco antes de la crisis las cosas eran perfectas pero ha subido ha vuelto el crecimiento y sin embargo el río sigue bajando bastante menguado por qué porque ha habido quien ha aprovechado la situación quien ha aprovechado la crisis para hacer una toma ilegal de recursos aguas arriba para drenar el río de los recursos y para embolsarse un caudal

de la riqueza que se genera esos son los famosos cambios estructurales que hemos vivido durante la crisis

y diciéndonos que esto es lo que hay se han ido imponiendo regulación tras regulación legislaciones cada vez más que hacían recaer sobre los hombros de la mayoría trabajadora el peso de la crisis y si cuando había sequía nos tocaba apretarnos el cinturón ahora que parece que está lloviendo ahora que hay crecimiento económico parece que nos sigue tocando apretarnos el cinturón porque las reformas estructurales persisten

no van a cambiar per sé no es suficiente con que pase el tiempo no es suficiente con quedarse esperando es necesario realizar políticas proactivas

con un producto interior bruto per capita de treinta y cinco mil euros el salario mínimo es de casi mil quinientos euros

de pib per capita el salario mínimo es de mil cuatrocientos aquí en euskal herria

tenemos un salario mínimo de mil cincuenta apenas unos puntos de diferencial

pero un treinta y tantos por ciento menos de salario mínimo la diferencia que hay

son prácticamente cuatrocientos quinientos euros de salario y quizás la diferencia que hay entre irún y hendaya es la que estamos viendo estos días

con el pueblo en la calle movilizado pidiendo cosas y con un gobierno

que por cierto sí que saca también a la policía a la calle pero lo primero que hizo fue decir vamos a ver qué es lo que está pidiendo esta gente y vamos a aprobar un paquete de medidas sociales eso hace la derecha en el estado francés claro que

francesa fue cortar la cabeza a un rey mientras que el deporte nacional en el reino de españa es chuparle las alpargatas a otro rey y así nos van las cosas y a otro lado de la muga porque es verdad que los últimos años los trabajadores y trabajadoras vascas han recuperado un poco un poco de poder adquisitivo y se ha reanudado un poco la negociación colectiva pero eso no ha sido bajo ninguna de los conceptos de ninguna manera por incidencia y por influencia de este gobierno de un gobierno que no solo ha dado la espalda a esa reivindicaciones sino que se ha opuesta en la mayoría de las veces frontalmente

los trabajadores y trabajadoras se ponen en pie para reivindicar sus derechos

de turno diciendo que esto perjudica la imagen del país

los trabajadores y trabajadoras están reconquistando de forma muy lenta y muy costosa espacios gracias a su lucha y mientras el gobierno no solo no les apoya no solo

directamente se alinea con la patronal y luego tenemos lo que tenemos

orkestra en su informe sobre la competitividad del año dos mil dieciocho decía

que con nuestro producto interior per capita somos la región número treinta y cuatro de entre las casi trescientos regiones europeas

con las que el instituto orkestra hace las comparaciones somos la quinta

sin embargo cuando se va a la renta disponible es decir no la riqueza que se genera sino la riqueza que realmente llega a los bolsillos de las personas en este país nos encontramos con que estamos en el puesto ochenta y ocho entre las regiones europeas entre las regiones avanzadas con las que nos queremos comparar

porque hay un problema de redistribución de la riqueza casualmente entre comillas casualmente la comarca de este país que mejor redistribuye la riqueza y que tiene una renta disponible más alta per cápita es debagoiena que es la cuna del cooperativismo donde las cosas

hay un problema de reparto de la riqueza y ese problema es un problema capital para este país estamos hablando hoy del salario mínimo del tamaño del plato de comida que se pone en la mesa del segundo colectivo de personas más desfavorecidas de este país los más desfavorecidos serían evidentemente aquellas que están en paro o en situación de exclusión

esta es algo a lo que no se le puede dar la espalda esto es algo a lo que no se puede decir que no es competencia

a lo que se le pueda decir que el gobierno vasco no puede hacer nada esto es una responsabilidad directa también de las instituciones de este país aunque no tengamos la competencia directa

vías legales y factibles para dar pasos en la dirección adecuada

hace unas semanas compareció aquí el viceconsejero de empleo y juventud a presumir de que el salario mínimo de los jóvenes de este país por primera vez había superado los mil euros a mí me viene a la cabeza aquello de cicerón o tempora o mores

ser mileurista era sinónimo de estar en las puertas de la exclusión ahora resulta que el mileurismo es el objetivo

en este país parece ser que el gobierno en lugar de querer transformar las cosas lo que quiere es

pero las cosas no van bien las cosas no van bien y el papel de este gobierno es que las cosas vayan bien el gobierno tiene una fórmula con la que afronta todos los problemas una fórmula doble el gobierno siempre está preocupado y confía en que pasen cosas

el gobierno está preocupado por que siemens compre gamesa y confía

el gobierno está preocupado por la situación de la naval y confía en que aparezca un inversor

y confía en que siga siendo empresa del país pero el gobierno vasco no está para estar preocupado y para confiar para eso están las madres y los padres para preocuparse

el gobierno vasco es el poder ejecutivo y el gobierno vasco está para hacer cosas el gobierno vasco no puede decirnos que está preocupado por los bajos salarios

para que pasen las cosas y yo como muchas veces digo no puedo exigir el éxito al gobierno vasco en sus proyectos pero sí puedo exigirles el intento y yo creo que el gobierno vasco el partido nacionalista vasco y desgraciadamente también el partido socialista

necesitados de esta sociedad negándose a avanzar hacia la instauración de un salario mínimo

cada uno tendrá que dar su responsabilidad pero creo que esto dificulta el que puedan mirar a la cara a estos colectivos eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

desde la coalición elkarrekin podemos la verdad es que pensamos la iniciativa y la transacción a la que hemos llegado con el grupo proponente con el grupo eh bildu es yo voy a decir creo que una muy buena iniciativa la razón por la que en cierto sentido podríamos sentirnos

no vaya a salir adelante puesto que solo va a tener el apoyo de los grupos que hemos

la parte izquierda políticamente hablando de la cámara pero a la vez creo que podemos estar satisfechos porque creo que es una iniciativa potente interesante y que afecta a las condiciones de vida materiales

trabajadora de nuestro pueblo yo no acabo de compartir demasiado la metáfora que nos ha explicado el señor casanova

haya bajado escaso en los últimos años no se debe a situaciones meteorológicas nosotros pensamos y así lo hemos explicado más de una vez que se ha establecido no solo en el caso de euskadi no solo en el caso del estado español en la última década se han establecido una serie de políticas deliberadas

de capital de la clase trabajadora a los capitalistas o a las clases dominantes o como quieran ustedes llamarlos

que en el caso de nuestro país han venido impulsadas fundamentalmente de la mano del partido popular pero en buena medida también de la mano del partido socialista obrero español en un primer momento

una nueva realidad socioeconómica una nueva realidad socioeconómica que se pretende

se instale de manera definitiva no comparto por lo tanto que se esperase que en algún momento el caudal del río volviese a bajar con fuerza la intención era precisamente dejar

trabajadoras y trabajadores dejarlo escaso para garantizar las tasas de beneficio del capital esta es una convicción

desde nuestra coalición pero efectivamente desde la izquierda tenemos que luchar y pelear

esa situación entre otras cosas tan siquiera porque somos conscientes que una sociedad sin un mínimo de cohesión social

y es cierto como ya se ha dicho por parte del señor casanova que la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido que han sufrido las y los trabajadores en nuestro país

y no lo décimos solo las fuerzas y organizaciones de izquierda y no lo dicen solo las organizaciones sindicales lo ha dicho en este parlamento en comisión

pues organismos como el ces organismos como el

poco sospechosos de ser organismos que actúen de parte de una o de la otra y además nosotros si no recuerdo mal la última vez tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente al ces cuando compareció en comisión y efectivamente nos decía que esa pérdida de poder adquisitivo

de capital de las rentas del trabajo a las rentas del capital por lo tanto no es un discurso izquierdista no es un discurso que solamente podamos suscribir

por eso a nosotros nos parece muy interesante una iniciativa como esta que establezca una serie de parámetros a la hora de fijar cuando menos

para que en nuestro país las clases trabajadoras puedan tener unos salarios dignos que son unos salarios acordes

y para que el conjunto de la sociedad pueda tener una cohesión social

una sociedad además creo que la iniciativa tiene pocas pegas luego escucharemos los argumentos tanto del partido popular como del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

para ser rechazada y en concreto yo exhorto al partido socialista

un redactado que pocos argumentos puede tener en mi opinión el partido socialista para rechazarlo con fórmulas además

para poder ser aprobadas me remito al texto de la redacción el parlamento vasco considera urgente compensar la pérdida de poder adquisitivo considera urgente compensar considera

considera es una declaración el parlamento vasco manifiesta que nuestra realidad socioeconómica y las recomendaciones de organismos europeos deberían

un salario mínimo garantizado que es una fórmula que nosotros incluíamos en nuestra enmienda

un salario mínimo interprofesional y en nuestra opinión no solo porque legalmente no pueda ser porque es una competencia estatal sino porque además por convicción

como medida de garantía de igualdad entre trabajadoras y trabajadores de diferentes puntos y de diferentes naciones del estado

es que además existen herramientas legales suficientes a través principalmente de la negociación colectiva para que en este caso una comunidad autónoma pueda establecer

no hubiera salarios por debajo de esa cifra el parlamento vasco solicita al gobierno vasco que muestre su apoyo a esta cuestión

a que utilicen los mecanismos legales disponibles para garantizarlo no les piden nada del otro mundo simplemente que utilicen los mecanismos legales los que ya existen para garantizarlos y finalmente el parlamento vasco considera la adquisición de competencias considera

que permitan construir un marco de relaciones laborales alineado con la realidad socioeconómica del país y establecer un salario mínimo superior al estatal porque como venía diciendo para nosotros es importante mantener también cohesión interterritorial y la solidaridad entre los diferentes territorios considera necesaria la adquisición por lo tanto todos los puntos de la transacción del texto que se va a someter a debate creo sinceramente que podían ser asumidos por esta cámara y creo sinceramente que podían ser asumidos por todas las organizaciones de la izquierda al menos

en esta cámara nosotros desde luego vamos a escuchar con atención los argumentos de quienes rechazan

iniciativa pero nos parece que no hay argumentos desde luego ni legales ni jurídicos para rechazarla simplemente va a ser una cuestión

aquí es perfectamente asumible y el gobierno vasco perfectamente puede asumir una transacción como esta no se le está pidiendo nada del otro mundo pero sabemos que al gobierno vasco

nunca dirigirse hacia

a la hora de establecer cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y sabemos que nos remitirán a que eso lo tienen que dirimir entre patronales y sindicatos y yo volveré a decirles como en tantas ocasiones que sí lo tienen que dirimir entre ellos ellos tendrán la última palabra

y que puede manifestarse políticamente haciendo esta serie de consideraciones políticas que dan pie a que como parlamento le digamos a la sociedad que necesitamos mejorar los salarios en nuestro país para garantizar las condiciones de vida de nuestra gente y para garantizar una sociedad que efectivamente tenga una cohesión social y que cuando hablemos de cohesión social no sea

no es tampoco una cifra inventada lo ha explicado también el señor casanova el porcentaje

está a la cola de europa y por lo tanto tenemos margen para mejorar los salarios y necesitamos mejorar los salarios de lo contrario

y que algunos pretenden que se establezca una clase trabajadora empobrecida que sea

algún compañero se ha dejado el boli se lo cierro para que luego lo pueda recoger bueno presenta eh bildu una

cuatro cuestiones porque partimos del texto original luego hay una transacción que no tenemos conocimiento de su texto definitivo por lo menos hasta que usted ha dicho ahora que tenemos una transacción nosotros intentamos llegar a un acuerdo ayer por la tarde no fue posible

que nosotros no compartimos ustedes igual sí nosotros no compartimos la proposición original

el salario mínimo en las contrataciones públicas el salario de convenio y el salario interprofesional vasco el salario mínimo interprofesional vasco justifica

y poner en vigor las medidas pertinentes utilizar las herramientas que tenemos para revertir la precarización laboral y cita a continuación como primera de esas herramientas la fijación del salario mínimo interprofesional y fíjense señores casanova y señor hernández

una coincidencia que en nuestro caso no parte solamente de coincidir en palabras desde una tribuna

parlamento vasco sino que la tenemos tan interiorizada que hace escasos tres meses tres meses el gobierno socialista liderado por el presidente pedro sánchez ha acordado la mayor

años un incremento del veintidós coma treinta por ciento

euros al año novecientos euros al mes si lo consideramos en catorce pagas el salario mínimo interprofesional es cierto afecta a los trabajadores y trabajadoras que perciben los salarios más bajos

en ciento sesenta y cuatro euros al mes esto va a beneficiar a dos coma seis millónes de trabajadores y trabajadoras el quince por ciento del total de los asalariados y es lo cierto que es un salario que sufrió una importante pérdida de poder de compra entre el dos mil diez y el dos mil diecisiete en esa historia que nos ha contado de los ríos que habían sido pinchados en la parte superior bueno pues puede ser que entre el diez y diecisiete se había pinchado también en este instrumento de cohesión social porque en este periodo las subidas nominales del smi fueron casi imperceptibles subieron a un ritmo

al año acumularon en ocho años tan solo un incremento de setenta y cuatro euros por lo que la decisión que se ha adoptado por el gobierno socialista de españa resulta absolutamente necesaria desde el punto de vista de la justicia social desde ese repartir el agua

hace necesario a que volvamos a recuperar ese cauce que la crisis

que descendiera ese es el instrumento que teníamos la izquierda la cámara la parte izquierda de la cámara creo que ha dicho el señor hernández y esa

izquierda en el congreso de los diputados que es donde tienen esta herramienta en el gobierno de la nación que es donde tienen esta herramienta es donde se ha utilizado no se puede discutir y eso es cierto que el papel que juega el smi es importante en cuanto a mejorar las condiciones

ni que deben seguirse dando pasos firmes para que nos podamos acercar a ese sesenta por ciento del salario medio que establece la carta social europea

estos mandatos y tampoco nos vamos a enredar porque luego lo van a intentar en debates estériles e interesados de quienes se han lanzado a criticar que se mejoren

ya las condiciones de las y los trabajadores que menos ganan al revés los socialistas lo que vamos a hacer es defender la necesidad de seguir incrementando el salario mínimo interprofesional y no solamente lo vamos a defender desde una tribuna sino que también lo hemos puesto ya negro sobre blanco y lo hemos incorporado en los ciento diez compromisos de gobierno para la próxima legislatura

a aumentar gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento del artículo cuatro de la carta social europea y las recomendaciones del consejo de europa es decir que alcance

que eso se tendrá que hacer de manera progresiva y es cierto y comparto con usted señor hernández solo queremos un salario mínimo interprofesional queremos un salario mínimo interprofesional para todos los trabajadores sin importarnos si el trabajador es gallego extremeño andaluz vasco catalán igual no diferenciamos ni clasificamos a los trabajadores que menos cobran y a los cuales protege el salario mínimo interprofesional por eso no entendemos tampoco la defensa de un salario mínimo

vasco creemos que el instrumento es otro y es otro para todos salario mínimo interprofesional y negociación colectiva que entraré después

ya la hemos debatido en este parlamento hace escasos dos meses

en todo tipo de contratación le decíamos entonces creo recordar que era a la señora ubera

dentro de sus competencias ha aprobado como han hecho también otros parlamentos

para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación que tiene un objetivo muy claro que es garantizar el respeto de los derechos laborales que asisten a las trabajadoras y trabajadores y son derechos que se recogen y ustedes lo saben

unas cláusulas que exijan a las contratas a todas las contratas el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por convenio colectivo aplicable

en el que podemos influir en el tema de los salarios y en su fijación

al portavoz de podemos de que está muy bien pero hay un refrán que dice utilizamos palabras pero hay un refrán que dice también que mucho predicar pero poco dar trigo

aquí predicamos aquí predicamos en el parlamento vasco

allá donde gobiernan ustedes están en gobierno en navarra comunidad autónoma con competencias supuestamente las mismas que les piden a este parlamento han aprobado

de cláusulas sociales yo la he leído ustedes me imagino que también saben dónde aparece el mínimo que hay que pagar en las contrataciones públicas en ninguna de las páginas en ninguno de los artículos por tanto nada que ver lo que hacen

saben perfectamente lo han dicho que otro de los instrumentos para garantizar el salario mínimo es el convenio colectivo es la negociación colectiva

no va a ser diferente creemos y defendemos que es en este ámbito de negociación colectiva entre los representantes de la clase trabajadora y los representantes de las empresas

en las que se deben de desarrollar los contratos de trabajo y eso es precisamente señores casanova y señor hernández lo que se ha hecho a través de este documento

aproximadamente siete meses en verano del año dos mil dieciocho el año pasado hay un acuerdo entre patronal y sindicatos a nivel estatal en el quinto acuerdo de negociación colectiva y aquí en su punto número cuatro que durante la vigencia del presente acuerdo que por cierto les voy a recordar está vigente durante tres años acaba de empezar su andadura este acuerdo entre patronal y sindicatos se establece que de manera progresiva se insta a establecer un salario mínimo de convenio

euros anuales eso en términos mensuales son mil ciento sesenta y seis coma sesenta y seis euros en un cómputo

sí hay que seguir en la misma senda sí se ha reactivado sí hemos mejorado algo sí lo reconocen incluso ustedes mismos ahora eso sí cuando la cosa mejora no tiene nada que ver con el gobierno procede por ciencia infusa

siempre son culpa del gobierno en fin un poquito más de ecuanimidad en las intervenciones también se tendría que hacer la tarea ahora es clara

cierto pero también las centrales sindicales todas las centrales sindicales

corresponderá a los poderes públicos y lo que va a corresponder a este gobierno es coadyuvar a que esto sea posible

porque hemos tenido oportunidad de debatir sobre ello ustedes fundamentalmente eh bildu denosta el marco de relaciones laborales vasco que tenemos y nosotros en cambio lo defendemos

señor casanova usted sabe que no está en manos de este parlamento ni tampoco de este gobierno promulgar

ni por decreto ni una subida de salarios ni una fijación del salario mínimo interprofesional ni un salario mínimo de convenio ni un salario garantizado lo sabe y lo conoce

pero insiste por tanto cuál es el objetivo real de la reiteración de esta propuesta una y otra vez a este parlamento cuando usted sabe cuáles son los argumentos y cuáles son

que los salarios mínimos son una herramienta potente de cohesión social porque contribuyen a prevenir la pobreza y fomentar

salarial más dinámico y eso contribuye también a la competitividad pero nuestro compromiso va a ser seguir impulsando los instrumentos legales que lo hacen posible

del estado español y por otro lado seguir fomentando e impulsando los ámbitos de la negociación colectiva
para eso ustedes saben que cuentan con nosotros eskerrik asko castelo andrea

nuestra posición a pesar de que ha habido un esfuerzo en llegar a un acuerdo pero cuando alguna de las partes no renuncia no es flexible pues le pone difícil al resto de partes poder consensuar algo el compromiso de este grupo parlamentario y del gobierno vasco ha sido

respecto a una subida salarial con carácter general pero eso sí en el ámbito de la negociación colectiva y así lo volvemos a recoger en nuestra enmienda igual que lo hemos hecho en momentos anteriores y la actitud o el papel

ha sido claro en este sentido incluso ha sido pionero a pesar de las críticas en este mensaje y después otros se han sumado se han ido sumando a este mensaje compartimos así que los salarios deben ajustarse a la realidad socioeconómica de cada territorio en este caso de la nuestra pero lo que no compartimos en absoluto

por un lado porque no debe sustituir a ninguna de las partes de la negociación colectiva patronal y sindicatos no debemos suplantarles ni tampoco condicionarles

en este caso lo disfracen jueguen con las palabras y cuando en un principio se hablaba de un salario mínimo interprofesional ahora es un salario mínimo luego es un salario de referencia

lo que quieren la pretensión es condicionar esa negociación colectiva

que desde luego el llegar a acuerdos corresponde no en este caso al gobierno sino a las partes que son patronal y sindicatos

la evolución de la economía hay margen para la subida de sueldos entendemos que sí puede ser generalizada pero no tiene por qué se universal ya que hay que no nos podemos olvidar como

que ha habido una fuerte crisis en este país en lo que todos y todas

y por otro lado la situación en este momento de las empresas pues es muy plural habrá empresas que podrán llegar a más que de hecho están llegando a más a subidas superiores y otras pues que están

la esencia o la característica el tejido empresarial de este país que se basa fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas así será en la negociación colectiva esas empresas con sus trabajadores

podrá haber subidas pero tendrá que ser ese el ámbito en cualquier caso ustedes insisten en fijar desde el parlamento una cifra y esa cifra es mil doscientos euros en este caso

que no se trae esa cifra no está fundamentada con el rigor suficiente para una cuestión tan seria

igual que podría ser otra pero entendemos que requiere un rigor mayor cuando además inicialmente se hablaba de una cifra neto mil doscientos euros en catorce pagas netos

y la diferencia en la cuantía total es sustancial con lo cual lo que nos indica es que lo importante para ustedes era la cifra el eslogan mil doscientos euros no están les daba igual la cifra total final

eslogan que no sé si será porque estamos en campaña pues ustedes insisten en ella y eso cuando escasamente dos meses se ha puesto en marcha un salario mínimo de novecientos euros que mayoritariamente ha sido reconocido como un avance incluso algún partido presente en este parlamento lo ha firmado entonces nos sorprende que ahora haya el salto a intentar establecer como

dicho sea el paso en euskadi en este momento se superan mayoritariamente los convenios ya superan esas cifras

pero la situación es plural también los salarios la tendencia a los salarios ha sido al alza

poder adquisitivo y este parlamento ya se ha posicionado a favor de la subida salarial ya se posicionó

que usted en aquel momento el acuerdo del diecisiete de mayo del diecisiete lo calificó como un éxito como un buen acuerdo cuestión que parece que unos días más tarde pues ya no valía nosotros consideramos que en aquel acuerdo se reivindicaba

se establecía como base el acuerdo de estructura del diecisiete de enero del diecisiete que debía ser la base

para la negociación colectiva contando prioridad al ámbito nuestro al ámbito vasco

principalmente el de estructura está en vigor y ahora corresponde desde entonces y sigue en vigor corresponde a los agentes sociales dotarle de contenido lo que hace falta es que se firmen convenios lo que hace falta son acuerdos lo que no es necesario es que continuamente se traigan a esta cámara acuerdos que vayan superando poquito a poco o que pretendan superar lo anterior la base está ahí los instrumentos están ahí

y a esos instrumentos son a los que hay que dotarles de contenido y no vemos que sean necesario nuevos acuerdos claro que será legal que haya un nuevo acuerdo no

y por otro lado no le veo a usted a ustedes dirigirse con la misma insistencia a todas las partes

vascas pero no les vemos dirigirse con la misma determinación

y en lo que al gobierno vasco corresponde efectivamente el gobierno vasco es responsable es responsable en lo que le corresponde

sin duda la tiene ha sido pionero en el mensaje de subida de sueldos y por otro lado en lo que en este ámbito le corresponde isiltasuna mesedez es coadyuvar
a las partes a que puedan llegar a un acuerdo fomentar el diálogo fomentar los lugares de encuentro permanente de diálogo permanente esa es la labor ese es el papel

al gobierno y ahí la labor del gobierno vasco es intachable e incuestionable y por otro lado en su ámbito en el que le corresponde la subida ha habido una puesta clara continua en los últimos años desde que se ha podido

en el sector público se ha ido siempre a los máximos legales ahora hace un mes se ha aprobado una subida salarial del dos coma veinticinco por ciento además de las aportaciones a itzarri

la suya no es tan clara porque cuando aquí vienen lo que realmente es competencia de este parlamento que son la aprobación de las leyes presupuestarias donde

ustedes nunca la aprueban le piden compromiso y responsabilidad al gobierno pero cuando

una competencia intachable o indudable de este parlamento ustedes siempre

para no comprometerse por lo tanto y en lo que se refiere a la contratación

ya tuvimos como ha dicho la señora castelo tuvimos un debate en ese sentido hace escasamente cinco meses el veinticinco de octubre del dieciocho y yo me remito a mi posición en aquel debate en cualquier caso insistir que no es posible fijar

interprofesional desde la contratación pública es una modificación de legislación laboral que nos guste o no nos guste efectivamente no nos gusta no tenemos la competencia

ya lo dijimos el veinticinco de octubre y lo volvemos a decir por lo tanto entendemos que la

intención de la iniciativa pues era un titular un titular fácil porque las vías para conseguir eso que ustedes piden

no de ley sino deben encontrarse en otros ámbitos eta besterik gabe eskerrik asko

el señor casanova en un alarde de intuición ha deducido que nosotros íbamos a votar en contra de su propuesta

porque hay algunos que somos responsables y sí nos preocupan los trabajadores que cobran menos dinero que otros a usted no y a podemos tampoco a ninguno de los dos por eso la ha traído

que no deja de tener su gracia con algunos hombre señor

incoherentes absolutos ustedes han pactado en el mes de diciembre un salario mínimo de novecientos euros y viene aquí ahora y pide mil doscientos pero usted pacta donde está la competencia para hacerlo y aquí pide mil doscientos que también lo trae porque sabe que no se va aprobar

qué buenos son los de la extrema izquierda que defienden a los trabajadores que menos ganan qué nos propone en la siguiente propuesta que nos traen y que el gobierno vasco y todas las administraciones públicas a la hora de subcontratar o contratar con alguien

como el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos que son los que pagan

qué más da verdad porque a ustedes les da igual y luego por último

considero que el salario mínimo en españa tiene que ser uno para todos pero si usted ha firmado porque acabo de recibir la transacción una transaccional pidiendo lo contrario

pidiendo lo contrario oiga literal dice incluida la capacidad

tener la capacidad de tener un salario mínimo

usted firma unas cosas y aquí dice otras no sé a quién le quiere engañar porque algunos leemos

y luego aquí a todo el mundo se le llena la boca con la negociación colectiva todos defienden la negociación colectiva y en la transacción que traen ustedes

no sé dónde queda la negociación colectiva si ya les dicen ustedes lo que tienen que firmar esta es la defensa de la negociación colectiva que hacen

a ver la enmienda de los representantes del gobierno tiene su cosa tiene su cosa porque aquí también se defiende la negociación colectiva desde los grupos que apoyan al gobierno hombre señora castelo negociación colectiva era esto

sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional en toda españa hasta el año dos mil veinte no duró un año porque la negociación colectiva de la izquierda fue esta el señor sánchez y el señor iglesias firman

lo que ellos estiman conveniente al margen de sindicatos y patronal

con el mismo discurso que hemos oído aquí hoy y cuál fue el efecto porque encima tienen ustedes un secretario de estado que algo sabe porque el mismo día que aprobaban

romper el acuerdo de patronal sindicatos y gobierno de la subida del salario mínimo ese mismo día el señor octavio granados secretario de estado de la seguridad social dijo

y restringir la creación de empleo sabe lo que pasó a los diez días el primer día que entró en vigor ese decreto con esas personas que son las que menos ganan

hábil de enero el doble que el peor mes de enero en la historia de los últimos quince años

ese fue el primer efecto

y sabe cuál ha sido el segundo efecto en los meses siguientes que la contratación indefinida se ha desplomado

por cierto estaban avisados hasta por el banco de españa eso ha sido el efecto que hemos tenido en estos tres meses desde que se aprobó esto en contra de

claro y digo que es curiosa su enmienda

pero si ustedes se lo han cargado con esto se lo han cargado ese acuerdo

en esto en esto se lo han cargado primer punto dice que les parece fantástico y que se lleve a efecto pero si la ceoe ya les ha dicho oiga

rompen unilateralmente los acuerdos pues ya no hay acuerdo pues muy bien fantástico es lo que han conseguido

y la patronal confebask y nos dicen que ese fantástico oiga y un año después de firmarse ese acuerdo

que a la porra el acuerdo confebask ha dicho

y ustedes nos dicen que es la base de qué si los propios que lo firmaron están diciendo que ni se cumple ni esperan cumplirlo sino que además hay dos sindicatos que dicen que lo van a atacar y ustedes

qué de qué esta no es la forma de preocuparse por lo que menos tienen o luego traer aquí iniciativas

favorecer el comercio minorista que por cierto es el más perjudicado en los despidos con las subidas del salario mínimo señor casanova y señor hernández que luego aquí nos traen iniciativas para defender el comercio minorista

son las que se cargan el empleo en ese sector en palabras del señor octavio secretario de estado del partido socialista del gobierno del partido socialista apoyado por podemos hoy nos han venido no sé si esto es campaña precampaña o qué es

los que pactaron el salario mínimo de novecientos euros para toda españa nos vienen a decir que ellos quieren mil doscientos oiga haber pactado mil doscientos

que no sé por qué hay que irse al mínimo que ustedes entienden que tampoco es mil doscientos

es mil ciento sesenta sí es mil ciento sesenta si es que lo firmaron

ya se decía que había que llegar a ese sesenta por ciento recomendado en europa

sí claro claro que lo he leído mil ciento sesenta a nivel del estado español porque se habla del sesenta por ciento del salario

y que el salario mínimo según la carta social europea se tiene que referenciar al salario medio

y no porque seamos vascos y vascas más guapos o tengamos más derechos

tenemos salarios vascos porque tenemos precios vascos porque las casas valen a precio vasco y porque la compra vale a precio vasco entonces tenemos que adaptar al nivel de vida realmente existente el salario mínimo ya que he empezado con usted señor damborenea

de la mesa una documentación remitida al señor mariano rajoy brey usted no firmó el acuerdo pero se le remite un acuerdo tomado en este parlamento hace cuatro años

a desarrollar las medidas necesarias para situar el salario mínimo interprofesional en nuestro país en el sesenta por ciento del salario medio nacional tal y como establece la carta social europea con el acuerdo del partido socialista sesenta por ciento del salario de acuerdo a la carta europea eso es lo que estamos pidiendo hoy y claro también me ha pillado la señora larrauri que le cambio el nombre a las cosas para poder hacerlas usted me ha pillado es que lo quiero es que el salario mínimo aquí sea mil doscientos me ha pillado esa maléfica intención

y como no podemos hacerlo en base al establecimiento de un salario mínimo interprofesional

buscamos vías lo que ustedes buscan son excusas esto no son subterfugios esto es buscar recovecos en la legalidad para hacer cosas que queremos hacer

con una transaccional en la que ni siquiera por guardar las formas

con una transaccional que no tiene nada que ver ni con el derecho a decidir ni con el planteamiento del país del pnv con nada ustedes se limitan a constatar la imposibilidad de hacer las cosas nos piden que apliquemos el cuarto acuerdo estatal de negociación colectiva para ganar esos catorce mil euros anuales lo que significaría los mil ciento sesenta y seis euros a los que hacía referencia

actualmente el salario está en mil cincuenta prorrateando las catorce pagas que suponen los novecientos el acuerdo estatal al que ustedes nos remiten propondría que para el dos mil veinte y si las cosas van bien porque no es vinculante estaríamos en mil ciento sesenta y seis

para la ciudadanía de este país acorde con sus necesidades y con su nivel de vida y ustedes ni están ni se les espera ustedes tienen un catálogo una forma aquí está el señor

de la intervención podría llamarse oda a un lehendakari ausente

en los últimos seis años me decía el señor grajales que claro yo elogiaba a los que estaban atrás el casanova del futuro que elogiará al señor yo no lo sé como dicen en big bang theory casanova del futuro si están los viajes en el tiempo inventados aparece aquí y dime que estoy equivocado no verdad

pero es que vienen unos que hacen buenos a los anteriores comparado

con la nada que supone este gobierno con la política somnífera

con no hacer nada ante los problemas es que están haciendo un estadista a patxi lópez y a ibarretxe ya solón

porque este gobierno está absolutamente paralizado que ante un problema como los salarios se limiten a encogerse de hombros y a decir que no hay competencia en vez de buscar fórmulas

es una auténtica inhibición es un reflejo de su programa de gobierno de sus compromisos de legislatura

a transformar las cosas qué es lo que proponían en el ámbito del empleo bajar del diez por ciento que es lo que todas las previsiones previsiones no propuestas o estrategias previsiones decían que iban a suceder por

pero qué se decía de la calidad del empleo qué se decía de la calidad de los salarios nada y qué es lo que está dispuesto a hacer nada ustedes tienen un catálogo de gobierno un catálogo de excusas

es culpa de madrid si hay que hacer algo no tenemos la competencia

que pone pegas a todo estamos en la pinza hoy sí que ha habido una pinza aquí

pero una pinza de freno una pinza de freno en los derechos de las personas de este país una pinza conservadora constituida por el partido popular el partido socialista de euskadi

les pido que no me cuenten señores del partido socialista lo que ha hecho el psoe en madrid

de los salarios porque las propuestas que se han traído hoy aquí que se han puesto encima de la mesa por parte de euskal herria bildu y de podemos al que aprovecho para agradecer su compromiso son propuestas factibles y son propuestas necesarias no sean una pinza conservadora

hemos venido con propuestas para un pacto de la energía hablamos hoy de salario mínimo vamos a venir con las deslocalizaciones ayer un día cualquiera en esta cámara hablamos de lindane

estudiantes de predoctorado a la élite intelectual del país

y cuando viene esa juventud más preparada de la historia a decir qué condiciones laborales tienen dicen que ni sueñan con tener mil doscientos euros que están absolutamente precarizados

ustedes se encogen de hombros se pasan la pelota unos a otros miran se desentienden y no hacen lo que en el marco de las competencias y de lo legal es posible hacer por mejorar

mi bolígrafo anteriormente que creo que no

que gracias por no llevarte el bolígrafo vamos a ver yo si fuera el grupo proponente si fuera el señor casanova igual pediría un receso porque

no entiendo que puedan no estar de acuerdo con la transacción

que el partido socialista no hubiera podido leer la transacción con anterioridad al inicio

por eso si la iniciativa hubiera partido de nuestro grupo pediría una recesión porque ustedes afirman que están de acuerdo

los salarios se tienen que adecuar a ese índice del sesenta por ciento del salario medio y sus socios del partido nacionalista vasco

realidad socioeconómica del lugar y ambos

de cuestiones a que se concreten en el ámbito de la negociación colectiva

creo que a grosso modo es lo que está diciendo la transacción

donde efectivamente los agentes sociales en euskadi tienen competencias perfectamente establecidas para establecer una serie de salarios mínimos podemos llamarlos como queramos sabemos que no podemos llamarlo salario mínimo interprofesional porque es otra coso

para a través de la negociación colectiva y a través del acuerdo interprofesional

a través de ese mecanismo se puede hacer efectiva esta cuestión de un salario mínimo que nosotros hemos llamado garantizado

en euskadi porque efectivamente yo comparto con el señor casanova que la realidad social de almería por poner un lugar al azar y la realidad social de bizkaia no es la misma y que el coste de la vida

no es el mismo nosotros y reitero desde luego ninguna intención de intentar acabar con el salario mínimo interprofesional en el estado español nos parece una conquista de la clase trabajadora en su momento que hay que preservar y para nosotros no es una contradicción

con la posibilidad de que en euskadi acorde a su realidad y al coste de vida que tiene que soportar la clase trabajadora en nuestro país

vía negociación colectiva que es perfectamente legal un salario

como quieran debajo del cual no se pueda pagar a las y los trabajadores que además sabemos que no sería suficiente porque desgraciadamente muchísimas y muchísimos trabajadores en este país no están cubierto

por lo tanto aun y todo habría trabajo por hacer pero no es una contradicción y se puede hacer perfectamente y efectivamente

sabemos perfectamente que son los agentes sociales los que tienen que acordar pero el parlamento y yo insistiré siempre

opinión el deber de marcar posiciones políticas sobre lo que cree positivo y además lo hace y los diferentes grupos políticos y partidos políticos

emite opinión sobre cuestiones que se tienen que negociar en el ámbito de la negociación

y desde luego la coe cuando rompe acuerdos lo hace como excusa porque ese salario mínimo que nosotros hemos pactado con el gobierno socialista en madrid que el gobierno socialista no estaba dispuesto a pactar un salario mínimo de novecientos euros en un principio

y la coalición unidas podemos el grupo confederal en el congreso

eso no rompe ningún acuerdo de negociación colectiva que marca un horizonte de aquí a unos años era un acuerdo para comenzar con esa subida importante en un momento donde los salarios están muy

un nivel de vida digno en el conjunto del estado y en el caso de euskadi la cifra no es aleatoria ya se han explicado las razones sesenta por ciento de salario medio comunidad porque además el propio gobierno vasco reconoce que por debajo de ese salario estamos hablando de sueldos de pobreza así se recoge en la encuentra de pobreza y bienestar social

termino ya por lo tanto nosotros exhortamos al grupo proponente a que si tiene a bien receso y tal vez lleguen a un acuerdo porque la iniciativa es buena y la iniciativa

al menos por el partido socialista en nuestra opinión eskerrik asko

no insista en dejárselo porque al final se lo quitan cójalo

ya les había advertido en mi primera intervención que alguno bajaría

manipularía datos y hablaría de los males del infierno que significa subir el salario mínimo

y lo voy a mantener en la segunda porque no me merece la pena no enredarme en esos debates en las que los pestes de los poderes económicos

los argumentarios pues en fin no merece la pena que guarde gaste ni dos segundos más con ello la única diferencia que hay entre el partido socialista y el partido popular

digno y a usted esa dignidad le resulta irrelevante a usted le da igual si el salario mínimo son seiscientos euros

que tenemos con nosotros con lo cual en fin negociación colectiva es lo que ustedes destrozaron con esa maravillosa reforma laboral que hicieron no a la ultraactividad de los convenios no a la garantía de las condiciones laborales de las y los trabajadores y no al equilibrio en la negociación entre partes y eso lo sabe usted

de todas formas también es cierto que yo reconozco que en este momento aquí podemos estar haciendo seguramente que es por interés yo comparto con la señora larrauri que alguna intención tiene

entonces no le extrañe si esto le resulta soporífero vamos nos resulta soporífero incluso cuando tenemos que preparar el propio discurso los que venimos a intervenir porque ya no sabemos muy bien ni cómo enfocar una cosa que ha venido cinco veces

porque como usted nos han puesto los mil doscientos por trozos primero para jóvenes luego para desempleados luego para contratados públicos luego para población en general luego para predoctorales vamos que por cierto

creo que fue no sé si ayer exactamente también gracias a un gobierno socialista al que por cierto no le tiemblan las piernas

yo no sé cuándo hay un acuerdo si es una cuestión del que lo pide o al final del que lo acepta o es de los dos del que lo acepta y del que lo pide pero al gobierno socialista en el gobierno del estado no le han temblado las piernas para acordar

del salario mínimo interprofesional a novecientos euros en el dos mil diecinueve ni le van a temblar las piernas

hasta alcanzar el compromiso del sesenta por ciento que dice la carta social europea yo no sé si a ustedes les tiemblan las piernas haya donde gobiernan aquí cerquita en navarra junto con estos señores porque aquí me piden los mil doscientos euros en la contratación pública y a ninguno de los dos les he escuchado aquí rebatirme

en aquellas contrataciones que hace en la comunidad foral de navarra entonces sí que es verdad que aquí igual

otros utilizan subterfugios pero lo que ustedes no hacen es repartir trigo allá donde pueden solo predican allá donde no tienen absolutamente ninguna responsabilidad y eso es en sí mismo irresponsable es irresponsable venir aquí y sabiendo además que ya les hemos dado nuestros argumentos por lo tanto saben ustedes que no van a tener la mayoría

de origen o tal y como la han transaccionado no la había leído pero ahora si he podido leerlo yo le puedo decir que no la puedo votar tal como la tiene redactada porque me dice que quiere

al modelo productivo de cada territorio de cada territorio de cataluña del país vasco de andalucía no yo quiero uno para todos los trabajadores y trabajadoras

en la comunidad autónoma vasca nosotros queremos un salario garantizado que ya existe los términos no es un problema de términos eh el salario garantizado y el salario de convenio son términos que se utilizan habitualmente en los convenios colectivos

en eso pero es que les he recordado que acaban de firmar un acuerdo para llegar

anuales mil ciento sesenta y seis euros al mes patronal y sindicatos denles

a que lo puedan trasladar a los convenios colectivos la media de negociación de los convenios colectivos y lo tenemos por los informes que se nos han presentado en esta cámara es de más de trescientos sesenta y cinco días

les queremos enmendar la plana y decirles que deben alcanzar uno superior hombre podríamos ir progresivamente si hubiesemos partido de aquello que fue lo que le ofertamos al señor casanova

en un salario mínimo de convenio no ha sido posible ustedes juegan a otra cosa y en ese juego que por cierto

la competencia de la fijación de salario mínimo interprofesional al país vasco

para cualquier trabajador sin que se le pueda clasificar por aquel lugar en el que había nacido eskerrik asko

eskerrik asko berriro ere bueno que el partido nacionalista vasco y que el gobierno vasco se quedan en el inmovilismo

que no adoptan compromisos que no que no señor casanova y señor hernández que no que el gobierno vasco ha apostado desde el principio que ha sido pionero que el señor

pionero en pedir una subida una subida general salarial pero que tuvo muchas críticas y que ustedes se sumaron posteriormente a ese mensaje

es inequívoco pero es que la solución está en otro lado que ya existen los instrumentos que está el acuerdo

que lo que hace falta es firmar más convenios que las partes que no es el gobierno firmen y usted no se dirige con la misma contundencia a esas partes

decía que habían firmado un acuerdo sin complejos pierda ahora los complejos otra vez pierda el complejo y diríjase a quien se tiene que dirigir porque la ciudadanía vasca se lo agradecerá porque la ciudadanía vasca necesita los trabajadores vascos necesitan más convenios para que siga mejorando el empleo para que haya más empleo de calidad y ese es el mensaje

este gobierno no se queda en los mensajes como ustedes se quedan este gobierno actúa lleva actuando durante cuarenta años

ustedes sí que ni están ni se les espera ni aquí ni allí en ningún sitio que pueda ser que la ciudadanía vasca pueda obtener un beneficio de su labor en ningún sitio y la cuantía de mil doscientos euros

ha cambiado de neto era neto ahora ya no es neto eran catorce pagas no querían hablar de una cantidad total porque querían el mensaje mil doscientos euros y

entre neto y no neto es importantísima y a ustedes les ha dado igual renunciar al neto

y que eso requerirá un mayor análisis que bien

pero que eso requiere otro estudio mayor rigor señor casanova y la posición de elkarrekin podemos me sigue sorprendiendo se lo dije señor hernández el veinticinco de octubre

pero la verdad es que lo sigo sin entender ustedes explican que sí que novecientos euros en el estado

seguimos sin entender su postura por mucho que de argumentos que intente dar argumentos yo veo una incoherencia clarísima y desde luego

y en cuanto a cosas prácticas ustedes se quedan continuamente señor casanova en los discursos teóricos

pierdan pierdan los vértigos en la negociación presupuestaria

del gobierno con una cuantía muy elevada para fomentar el empleo y en parte se recogía lo que ustedes hoy aquí dicen sí y usted lo sabe sí pero ustedes solo querían hablar de una cosa de pensiones sabiendo que esa no es la competencia

les venció el vértigo o no sé qué y no han sido capaces de dar nada de lograr nada para esta sociedad para la sociedad vasca ustedes

lo dudo mucho habrá que verlo en cualquier caso este gobierno va actuar va a seguir actuando con responsabilidad y trabajando para que

en este caso en concreto en el empleo eskerrik asko eskerrik asko larrauri

señor casanova salarios vascos precios vascos los salarios vascos son mayores que en el resto de españa porque los precios son mayores que en el resto de españa o los precios son mayores que en el resto de españa porque los salarios son mayores que en resto de españa que fue antes el huevo o la gallina

cuando usted dice el salario medio del país llegara al sesenta por ciento

siento comunicarle que esa normativa europea

para los estados miembros de la unión europea españa es ese país y la media de españa es la que en fin hay que llegar

coincidir en un objetivo podemos coincidir en llegar a un objetivo que es llegar a ese sesenta por ciento podemos

el pleno empleo estable y de calidad el problema no es el objetivo el problema es cómo se llega destruyendo

de llegar a eso destruyendo el empleo estable es una fórmula buena esa es la que usted nos ha propuesto

señor sánchez nosotros no estamos por la labor de eso ya le he dicho nosotros sí defendemos que la gente pueda trabajar un empleo estable y de calidad el señor hernández me dice el salario mínimo tal usted ha afirmado tener un salario mínimo distinto del de el estado

y sí ustedes rompieron este acuerdo sabe quién es ese de aquí un tal unai sordo no sé si les suena de comisiones y un tal pepe álvarez sí ustedes rompieron este acuerdo señora castelo el salario digno es lo que le diferencia al psoe del pp a ver

y el pp aquí se pactó un salario digno cosa que ustedes rompieron digo no sé si es más digno que doscientos setenta mil se vayan al paro que es lo que consiguieron el día dos de enero

su subida del salario mínimo a ustedes el empleo les da igual

con efectos demostrados a lo largo de los últimos veinte años o sea estamos acostumbrados

unos sacan unos otros sacan otros yo le voy a recordar algo por ejemplo se habló de las inversiones

en las depuradoras y algún representante de su partido dijo que es que como no se habían aprobado presupuestos nuevos oiga pero es que el vigente

me quiere usted decir los viernes chachis del señor sánchez qué partida presupuestaria y qué presupuesto tiene que los ampare

mire zapatero tardó siete años en quebrar españa

es capaz de superarle este señor en un año es capaz de llegar a quebrar españa y por lo tanto tenemos la oportunidad de evitarlo
dentro de un mes eskerrik asko damborenea jauna

berriro legebiltzarkideok traemos a debate una iniciativa

intentando poner el foco en los accidentes graves y muy graves y aquellos que acaban con resultado de muerte de trabajadoras y trabajadores dos años después ya de haber escuchado

alonso afirmar que el noventa y nueve por ciento de los accidentes laborales graves que se producen en euskadi en nuestra comunidad son evitables y entre ellos por lo tanto los accidentes con resultado desgraciado

tan cierta como categórica y contundente y por eso ante una afirmación así

por qué no somos capaces de evitar algo que décimos que es evitable y terrible algo evidentemente no se está haciendo bien más allá de la distribución de responsabilidades que cada uno podamos hacer y que vayamos a hacer

pero algo no se está haciendo bien y creemos que es importante reconocerlo porque en nuestra opinión o no se están haciendo bien las cosas o al menos

lo suficiente cuando un par de años después de aquella afirmación seguimos teniendo una realidad dura en relación con los accidentes de trabajo y de manera especial en relación

vidas humanas accidentes irreparables los datos de accidentes laborales del año dos mil dieciocho

los accidentes laborales mortales en euskadi durante la jornada laboral han aumentado un treinta y seis por ciento respecto al año anterior estamos hablando de un

pérdidas de vidas humanas respecto a los veinticinco que tuvimos en el año dos mil diecisiete en horario laboral hay que añadirles otras tres muertes desgraciadas ocurridas in itinere

accidentes de trabajo estamos hablando de un total de treinta y siete personas que se dejaron la vida el año pasado en su puesto de trabajo en nuestra comunidad treinta y siete personas fallecidas en accidentes graves demasiados

evitable el noventa y nueve por ciento de los mismos en palabras como decía del propio director de osalan y en cuanto al número total de accidentes con baja también en el año dos mil dieciocho hubo un aumento de un uno coma cinco por ciento en euskadi

es decir pensamos que las cifras lo que están haciendo cuando menos

algo que no va bien para la seguridad y la salud en el trabajo en euskadi y que no quiere decir que pueda haber cosas en esta materia que se estén haciendo bien mal o regular no va bien pero nosotros hoy no queríamos venir a discutir de cifras y a entrar en la pelea de las cifras

nos hemos encontrado con cosas como que

muy mal estarían las cosas en este país si las cifras de siniestralidad laboral y de muertes en el tajo

fueran superiores a las de hace treinta años o estuvieran peor que hace treinta años no pretendemos discutir de cifras y esperamos que el debate no vaya

por ese recorrido porque nosotros al igual que otros grupos han manifestado

nosotros nos sumamos a esa afirmación desde luego no por retórica sino por convicción sincera de que detrás de cada muerte en el trabajo hay una doble desgracia la muerte en sí

en un accidente evitable como decíamos consecuencia de la explotación laboral en tu puesto de trabajo por eso y ante la evidencia de que no se

cuando el propio gobierno reconoce que el noventa y nueve por ciento son evitables presentábamos esta iniciativa que además pensábamos que podría tener un respaldo

lo hacemos para impulsar la labor del gobierno porque ese es una de los cometidos de la oposición en un parlamento

que es evitable en buena medida pero que no está siendo evitada para azuzar al gobierno a que haga más y mejor porque creemos que la situación y la cuestión lo exige sabemos además que estas preocupantes cifras no son consecuencia directa de la recuperación económica

tal y como en nuestra opinión demostraron diferentes agentes sociales en la propia comisión de trabajo

situación de precariedad generalizada en los empleos en nuestro país nuestra coalición siempre ha defendido así lo hemos mantenido en este parlamento creo que con coherencia

es la mejor fórmula para evitar la siniestralidad laboral hay una relación directa demostrada

precarias y la accidentalidad en el trabajo y pensamos que está demostrada también la situación de precariedad precariedad generalizada y que se extiende

por eso somos conscientes y también lo hemos defendido siempre de que la mejor medida la primera al menos que necesitamos para reducir la precariedad y por lo tanto para reducir la siniestralidad

las reformas laborales acometidas en los últimos tiempos que son las que han extendido la precariedad como característica predominante de los empleos en todo el estado y por supuesto también en euskadi

a esas reformas la última la del partido popular sin embargo desde euskadi desde este parlamento tenemos también que combatir la precariedad y de manera específica la siniestralidad laboral y más aun a la vista del fiasco que ha supuesto en nuestra opinión

laboral lo décimos porque llevamos diciéndolo en las últimas semanas que el gobierno sánchez ha sido incapaz de derogar una reforma laboral

llegar a la moncloa ni siquiera se ha atrevido con la reversión de las partes más lesivas de dicha reforma como nos dijo

instalado en la moncloa y es el mismo partido socialista

el competente precisamente en garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en nuestra comunidad autónoma algo que en nuestra opinión no se está haciendo con resultados positivos a la vista de la realidad y los datos que conocemos no se está haciendo

si el propio departamento si el propio gobierno si la propia osalan reconoce desde hace ya dos años que la mayoría de esos accidentes graves y muy graves y en concreto yo me refiero de manera especial porque creo que tienen especial

son evitables y no los estamos evitando porque la cifra ha aumentado pues pensamos que como mínimo no se está haciendo lo suficiente

y sobre todo mejoras que puedan llevarnos a la eliminación como objetivo

de los accidentes laborales graves y muy graves sabemos que sería una quimera plantear que con cualquier tipo de medida con cualquier tipo de política vamos a garantizar accidentes cero pero en otros ámbitos de la política diferentes administraciones se marcan objetivos cero

lo mismo por lo tanto nos parece importante que el objetivo sea accidentes cero en concreto lo que presentamos hoy es una iniciativa que propone fundamentalmente dos cosas en primer lugar que se haga un plan de acción que tenga como objetivo la erradicación de la siniestralidad laboral un plan en nuestra opinión

dejamos margen suficiente al gobierno porque prácticamente lo único que le décimos es que haga un diagnóstico y haga ese plan pero pensamos que debería ser un plan integral un plan que tiene que ser trabajado por el conjunto del gobierno ni tan siquiera solo por el departamento de trabajo

entendemos que es una cuestión de osalan que es una cuestión de inspección de trabajo que es una cuestión del departamento de desarrollo económico que es una cuestión de diferentes departamentos

un plan a elaborarse sobre la base de un diagnóstico como decía

en euskadi por sectores de actividad y con perspectiva de género es cierto que se hacen informes y es cierto que se hacen planes y es cierto que hay un marco dos mil quince dos mil veinte pero pensamos que en la situación actual

requiere esta situación que se le dé una vuelta y que haya un plan integral que el gobierno acometa esta cuestión con decisión sabiendo que lo que se está haciendo no está consiguiendo evitar esta tragedia y en segundo lugar

con el fin de garantizar la prevención y la protección a las y los trabajadores en las empresas de menos de seis trabajadores empresas que como saben ustedes

a tener representación sindical y que por lo tanto no tienen en la actualidad delegados de prevención por lo tanto aprobar esta figura

no es la única carencia hemos escuchado muchísimas carencias que nos han explicado los agentes sociales cuando han pasado por la comisión de trabajo pero esta es una concreta que además nos han

que se dirige precisamente a las pequeñas empresas que como muchas veces hemos oído en este parlamento son la mayoría de empresas del país y donde además son las empresas donde mayores riesgos hay porque son las empresas que mayor dificultad tienen para aplicar medidas de prevención en la seguridad y la salud

más allá de la mayor o menor voluntad que tenga cada una es más fácil aplicar las medidas y además

hay comités de empresas hay representación sindical y hay delegados de prevención que hacen su labor

y se preocupan de la prevención y de estar encima de la empresa en esta cuestión pensamos por lo tanto que esta es una buena medida para garantizar la prevención

la mayoría y las que más dificultades tienen creemos que se trata de una medida concreta sencilla y que se debería poner en marcha cuanto antes porque además de positiva cuenta con un respaldo sindical nosotros así lo hemos escuchado en la comisión de trabajo

de que los diferentes sindicatos y los diferentes agentes sociales también la patronal luego tengan visiones diferentes de cómo se tiene que llevar a la práctica pero nosotros

décimos cómo se tiene que llevar a la práctica eso compete también a la negociación colectiva y porque además tenemos experiencia en otras comunidades autónomas

pero existen comunidades autónomas donde mediante acuerdo interprofesional se ha aprobado esta figura y los gobiernos respectivos han suscrito decretos para que exista esa figura de delegados o delegadas

sectoriales bien así las cosas pensamos que es una iniciativa que ayudaría a la mejora de las políticas de prevención de seguridad y de salud en el trabajo

donde en nuestra opinión creemos que es evidente que no estamos consiguiendo evitar algo que reconocemos que es evitable el gobierno reconoce que se pueden evitar esos accidentes y debe reconocer

que no se están evitando y que por lo tanto hay que hacer cosas nosotros proponemos estas dos cuestiones y pedimos a los grupos de la cámara que la respalden porque pensamos que pueden salir adelante y pensamos que serían

para las mejoras de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora en euskadi lo hacemos desde nuestras competencias y daríamos un importante

en materia de prevención y seguridad en el trabajo para acercarnos a ese objetivo accidentes cero y para intentar evitar que nadie más pierda la vida en su puesto

sí gracias presidenta vamos a debatir sobre

erradicación de la siniestralidad laboral y a nosotros eso nos parece

la siniestralidad laboral no solo supone un gran perjuicio para las personas trabajadoras sino que también supone un importante perjuicio social

sanitario y hay que englobar al hablar de siniestralidad laboral tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales y es muy importante realizar un trabajo constante en aras a conseguir una reducción de la siniestralidad laboral

de la administración desde osalan e inspección de trabajo como también por parte de las empresas las mutuas los servicios de prevención los trabajadores en los últimos veinticinco años desde que se creó osalan el índice de incidencia lo que sí es evidente es que se ha reducido en nuestra comunidad autónoma vasca en más de la mitad índice que pondera

trabajadora eso es un hecho se pueden producir repuntes en cifras lo hemos visto

ha tenido una reducción del cero coma nueve por ciento pero no quiero entrar

en un debate de cifras estoy de acuerdo con el señor hernández que no es lo propio en el debate de hoy aunque sí tengo que

que en el año dos mil diecinueve tendremos un incremento importante de accidentes de trabajo pero por una sencilla razón porque desde enero de este año tras la reforma que se ha producido en el régimen de

que se ha realizado por parte del gobierno de pedro sánchez a partir de ahora a partir de enero de este año se van a computar también dentro de las cifras de accidentes de trabajo

este año se producirá al tener en cuenta esa variación un incremento de la siniestralidad laboral en cuanto a registros de la misma pero

por la reforma laboral del año dos mil doce del gobierno del pp las causas que pueden incidir en la siniestralidad laboral el señor hernández a puesto de manifiesto una de ellas el aumento de la temporalidad y la parcialidad de los contratos que generan un deterioro de las relaciones laborales y repercuten en la seguridad y la salud de los trabajadores

incrementos de cargas de trabajo y estrés también hay que poner de manifiesto la falta de formación e información adecuada en materia preventiva

preventiva por parte de las empresas que lo ven como un coste y no como una inversión falta de una verdadera cultura preventiva un aumento

la reforma de la ley de mutuas que las da un poder absoluto dando una primacía a los intereses económicos sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras incumplimientos del deber de coordinación una vigilancia de salud todavía muy generalista

es más difícil vigilar el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad se ha puesto de manifiesto que en euskadi la mayoría de las empresas son pymes y carecen de delegados

etcétera son factores que pueden incidir y que inciden dentro de la siniestralidad laboral y contamos con muchas pequeñas empresas con menos de seis trabajadores

de prevención y dentro de esta iniciativa también se hace referencia a la creación de la figura del delegado territorial y sectorial con el fin de garantizar la protección en el ámbito de prevención de riesgos laborales para los trabajadores y las trabajadoras en las empresas de menos de seis trabajadores en la actualidad aunque el artículo treinta y cuatro de la ley de prevención de riesgos laborales señala que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo solo

trabajadores la participación de estos se canalizará

representantes legales delegados de personal y dentro de los mismos de los delegados de prevención mi grupo parlamentario los socialistas vascos no vemos mal la creación de la figura del delegado territorial o sectorial en las empresas con menos de seis trabajadores pero su creación en todo caso consideramos que solo puede venir reconocida por dos vías o bien

trabajadores o bien por un acuerdo interprofesional entre la representación empresarial y sindical en ningún caso

por iniciativa exclusivamente del gobierno vasco de forma unilateral nosotros somos muy respetuosos con la autonomía de las partes y la creación de la figura de este delegado territorial o sectorial

solo puede ser acordada por la representación empresarial y sindical mediante un acuerdo interprofesional y la creación de esta figura ha de plantear

algunos sindicatos no la ven bien tampoco el grupo parlamentario eh bildu en la actualidad el debate está dentro ya de la mesa del diálogo social desde que se inicia

hasta ahora se ha andado ya forma parte y este debate forma parte de la mesa del diálogo social se propuso por parte de ugt dentro de la misma y confebask no lo ve con malos ojos por tanto

social la creación de este figura del delegado territorial pero es a ellos

les corresponde decidir cuándo y cómo se cree esa figura del delegado territorial mediante un acuerdo interprofesional

el acuerdo hasta el último momento y no ha podido ser porque

en la propuesta inicial del grupo elkarrekin podemos y en la enmienda transaccional se seguía haciendo referencia a la elaboración de un plan integral

de género con el fin de erradicar la siniestralidad laboral en euskadi y no estábamos de acuerdo porque ya se elabora un informe anual por parte de osalan donde se recoge todo lo referente a la siniestralidad laboral se diferencia por sectores

la perspectiva de género y además se elabora el plan de gestión anual que se discute en el seno del consejo general de osalan y en cuya redacción

los distintos agentes sociales incluyendo dentro de los mismos los sindicatos los empresarios y las cooperativas y además todos estos

tienen en cuenta y se tiene existe además la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo dos mil quince

por tanto no veíamos necesario teniendo en cuenta la existencia de todos estos informes del informe anual el plan de gestión y la estrategia vasca de la elaboración de un nuevo plan

de la figura del delegado territorial pero la enmienda a la totalidad que presentamos el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista hablábamos de trasladar su creación a la mesa del diálogo social donde entendíamos que tenía que estar y donde está

en la actualidad para que sea a través de ese acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal como se cree esa figura

la creación de esa figura le corresponde a las partes a patronal y sindicatos y probablemente llegarán al acuerdo de creación de la misma dentro de la mesa del diálogo social

nuestra enmienda a la totalidad donde se recoge y se remite esa referencia a la mesa del diálogo social que consideramos importante que es donde tiene que nacer y crearse en las condiciones y con las funciones que consideren las partes necesarias esa figura

por supuesto compartimos la preocupación por la siniestralidad laboral como lo hace el gobierno que ha hecho de la salud y seguridad en el trabajo una cuestión prioritaria y en ello está centrando

areagotu egin direla realidad dura y que nos apela constantemente porque no hay ningún número aceptable de accidentes laborales para nuestro grupo es una

hasta llegar a erradicarla si es que esto fuera objetivamente posible a este respecto debemos destacar el trabajo que se viene realizando en los últimos años por parte de la administración en el ámbito de la prevención con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de las personas trabajadoras

por eso no compartimos la imagen que ustedes nos trasladan de falta de compromiso de la administración en este ámbito ustedes han hecho una foto y como foto da una imagen de un momento

con esto no queremos obviar la realidad actual el objetivo debe seguir siendo disminuir la siniestralidad laboral y para avanzar en ello es fundamental disponer de información de información puntual adecuada y suficiente para medir y valorar qué es lo que se está haciendo bien y dónde es necesario

para que realmente se puedan focalizar los esfuerzos haya donde realmente es necesario en este sentido parecería que la proposición no de ley de elkarrekin podemos al plantear hacer un diagnóstico y a partir del mismo elaborar un plan incidiría en esta línea

que es innecesaria desde nuestro punto de vista ya que el gobierno vasco ya dispone de datos

un análisis de la situación y a partir de ahí se dota de herramientas de gestión que le permiten avanzar en el ámbito de la prevención de riesgos laborales

así osalan periódicamente publica datos en relación con todo lo que tiene que ver de accidentes laborales y enfermedades profesionales

edad sector de actividad entre otras variables datos a partir de los cuales se elaboran informes también periódicos sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales en los que está incorporada la perspectiva de género y se tiene en cuenta por supuesto multitud de variables

centrar la acción preventiva es decir se dispone de un diagnóstico de la situación

anual que recogen en su caso las acciones a abordar planes que como ya se ha comentado se debaten en el ámbito del consejo general de osalan y su contenido definitivo

por eso creemos que es una buena oportunidad para que en el marco de ese foro en el marco de ese ámbito los agentes sociales que en él participan

encaminadas a ir avanzando en la reducción de la siniestralidad laboral estos planes de gestión

dos mil veinte estrategia por cierto consensuada con los agentes sociales y que sin duda es fruto de claro compromiso del gobierno vasco con la salud y la seguridad laboral por tanto en el gobierno se dispone ya de un marco de referencia definido de instrumento que permiten avanzar en el objetivo de fomentar la mejora de las condiciones

que haga algo que ya tiene datos diagnósticos planes de acción con perspectiva de género y un marco general como es la estrategia vasca de salud y seguridad en el trabajo y esto es lo que planteábamos en nuestra enmienda de totalidad que el gobierno continuara en esta línea

que se ha planteado se centra en el ámbito de las empresas de menos de seis trabajadores

estratégicos ha puesto en marcha diferentes medidas para desarrollar actuaciones dirigidas a elevar el nivel de protección de salud y seguridad de las personas a través del ejercicio de por ejemplo de la inspección es verdad que hoy no es objeto de debate la inspección hemos tenido ocasión en varias oportunidades

para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de todos los actores que intervienen en la prevención de riesgos laborales

realizan constantemente visitas a empresas para comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales realizan una función importante también

para el cumplimiento de esta normativa eta beraz badauzkagu mekanismoak laneko ezbehar kopuruari aurre egiteko dicho esto coincidimos en la conveniencia de fortalecer la protección y seguridad de las y los trabajadores en seguir dando pasos en el cumplimiento de este objetivo en ese sentido

que contribuyan a mejorar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y por tanto garantizar los niveles de protección adecuados

de seis trabajadores pero no compartimos la propuesta de materialización que se propone para ello hay otro foro hay un foro como es la mesa de dialogo social a través del cual creemos que debe de tratarse esta cuestión y es más ya lo ha comentado la señora sánchez en estos momentos ya es una cuestión que está sobre la mesa

ahora que se ha reactivado esta mesa y en esa misma línea pues planteamos también nuestra enmienda de totalidad porque se está planteando que se impulse la creación

hay muchas cuestiones que hay que valorar hay que tener en cuenta muchas cuestiones que deberán de ser concretadas como a quién le corresponde la designación o nombramiento de estas personas

en estas empresas de menos de seis trabajadores cuáles deberían de ser sus funciones bueno cuestiones varias y múltiples

determinarlas son efectivamente los agentes sociales y como digo hay un foro adecuado para ello que es la mesa de diálogo social y además bueno pues se está en estos momentos tratando

no ha sido posible llegar a un acuerdo en relación con esta cuestión aunque le reconozco señor hernández la actitud que ha tenido para buscar ese acuerdo para intentar llegar a ese acuerdo pero a pesar de que hemos intentado buscar ese punto

de que todos los grupos coincidimos claramente en el objetivo común de ir caminando y avanzando

la disminución de la siniestralidad laboral compromiso claro en el que también está el gobierno eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías buenos días a todos me gustaría empezar

explicar la posición de mi grupo ante la iniciativa de elkarrekin podemos quedándonos con una foto fija

de la exposición que ha hecho el señor hernández y es decir hay accidentes laborales hay accidentes laborales dentro de la jornada laboral los hay en itinere los hay leves los hay graves y por desgracia los hay con resultado de muerte y hace pocos días teníamos

pero además si tratamos de ver cómo evoluciona esa foto fija

más en serio a tomar medidas en el asunto por qué pues muy sencillo porque el número de accidentes laborales crece podemos meternos en una guerra de datos en un bombardeo de cuales crecen cuales dejan de crecer en qué sectores e incluso dentro de euskadi por territorios históricos

la realidad objetivamente el número de accidentes laborales

si vamos a los índices nacionales pues nos encontramos que todo va más o menos en la misma media que estamos en función de los periodos

de evolución general pero la realidad es que efectivamente accidentes

es necesario tomar medidas y como es necesario tomar medidas no entiendo por qué los grupos que sustentan al gobierno no quieren ponerse manos nos han explicado las dos portavoces tanto del grupo nacionalistas vascos como el grupo socialista cuál es su posición y por qué

aceptar la propuesta que nos traía hoy elkarrekin podemos y que mi grupo no enmendó en ningún momento porque creíamos que en si misma era perfectamente asumible y pensábamos que iba a salir hoy por acuerdo unánime

nos dicen que los estudios los porcentajes se conoce que ya está que ya se está haciendo y que no pueden unirse a una iniciativa para que el gobierno tenga que hacer algo que ya está haciendo incluso

pero la realidad es que tenemos los datos estadísticos y aunque tuviéramos también las medidas correctoras porque nadie nos ha hablado de cuáles son las causas de ese aumento o simplemente no del aumento de la existencia de accidentes laborales y el crecimiento y aumento de las enfermedades profesionales no hemos hablado de causas solamente del dato empírico lo tenemos lo conocemos bueno como ya está lo dejamos ahí no algo habrá que hacer

sí y crece la situación y la situación empeora por lo tanto no es suficiente con lo que nos está haciendo a día de hoy el gobierno en esta

que se haga un trabajo estadístico inmediato completo por sectores por territorios por sectores de producción por sectores de población entre hombres mujeres diferenciemos cada uno de esos ámbitos incluso

de los mismos territorios históricos dentro de las ciudades de las localidades más pequeñas porque creo que todos esos datos

análisis más minucioso de esos datos nos pueden servir para encontrar las causas que motivan ese

y una vez que tengamos esos datos traigan ustedes el plan de choque porque nos dicen que ya se hacen planes anuales bueno pero no sirven esos como los famosos planes de empleo

específicos dentro de la población de los trabajadores vascos este nos hablan ustedes que es el gobierno de las personas debe ser de las personas mayores porque mire los jóvenes especialmente los muy jóvenes que tienen entre los dieciséis y los veinticuatro años son los más castigados en el incremento

de esos accidentes laborales y las mujeres sobre todo las vizcaínas y las alavesas son las que han sufrido un incremento más fuerte de siniestralidad laboral no es el caso de las guipuzcoanas pues debe ser el gobierno de las personas sí

más mayores porque los otros colectivos efectivamente están mucho más desprotegidos eso en cuanto a lo que es la primera parte de la iniciativa no hay ningún inconveniente en venir a esta cámara entendemos nosotros y así se lo vamos a pedir y espero que salga adelante con el apoyo del resto de los grupos para que el gobierno nos analice estos datos nos diga cuales son las causas y nos traiga un plan de choque inmediato en un periodo corto de tiempo para que lo podamos poner en marcha precisamente

con un aumento importante de accidentes de trabajo efectivamente como decía la señora sánchez porque ahora vamos a contabilizar los accidentes de los trabajadores autónomos

vamos a hablar de las empresas de las más pequeñas que es que resulta que son las más numerosas de las que tenemos en nuestra comunidad

la realidad es que estamos hablando de empresas de un solo trabajador de dos de tres trabajadores es donde efectivamente no existe representación sindical bueno pensando en ellas y pensando en los trabajadores autónomos nos tenemos que dar cuenta de que ahí se va a producir un incremento muy importante en la próxima estadística que es la que tendremos el año que viene si a eso añadimos y lo veremos la semana que viene la fuerte exclusión de empleo que las políticas que se están llevando a cabo desde madrid que nos están llevando

el consejero de hacienda a un enfriamiento un leve enfriamiento pero enfriamiento de la economía que va a suponer destrucción de empleo

porque cuando se destruye empleo lo que ocurre precisamente es que el empleo que se mantiene

de precariedad aumenta la siniestralidad dónde en los colectivos más afectados en los jóvenes en el empleo femenino etcétera

que se inste desde aquí a los agentes sociales a que se pongan de acuerdo para nombrar esa figura legal que ya existe con unas funciones

entre las partes podrán aumentar o disminuir o concretar la fórmula que tienen que elegir ellos para nombrar a esos delegados sectoriales o territoriales de prevención de riesgos laborales

no compartimos señora otamendi que esto se haga desde osalan con la creación dentro de la rpt de nuevos puestos de trabajo nosotros entendemos que tienen que ser

nombrados por los sindicatos bien sea a través de las mutuas patronales la figura que tanto representantes de los trabajadores como representantes de las empresas

se pueda poner en marcha esa medida que quizá no contribuya enérgicamente a la desaparición de los accidentes de trabajo pero algo positivo hará

y ese nombramiento tiene necesariamente que ser dentro de la mesa de diálogo social

efectivamente los que más nos interesan hoy en este asunto y no me estoy refiriendo a las centrales sindicales que en su afán por hacer política se olvidan de la representación y de los problemas de los trabajadores no me estoy refiriendo a que en esa mesa que está

quienes están presentes son las grandes empresas o las grandes asociaciones empresariales

son las microempresas y esas se quedan lejos de estas

representaciones o de estas grandes mesas no entiendo que el gobierno

la creación por sectores de la manera que los representantes de unos y otros consideren oportuno y dentro de la función pública pues yo sinceramente y se lo trasladé así al señor hernández al que agradezco los esfuerzos que ha hecho para tratar de llegar a un acuerdo no veo especialmente necesaria esa figura aunque tampoco consideramos que sobre o que sea perniciosa por lo tanto nos abstendremos en esa parte

de su iniciativa por lo tanto yo llamo a intentar llegar al acuerdo entre todos porque creo que el problema es grande

es negativa y sobre todo la perspectiva a un futuro inmediata es muy negra para todos los trabajadores y las trabajadoras de este país que se van a enfrentar con importantes

por lo que he escuchado en el debate creo que hay una mayoría en este parlamento que considera que sí necesitamos ese plan que nosotros proponemos

en este momento que no andaríamos tan desencaminados independientemente de que

haga sus informes anuales de que efectivamente haya una estrategia vasca dos mil quince dos mil veinte que ya la mencioné intervención la cuestión es como decía al principio de mi anterior intervención es que si todos reconocemos y el gobierno en especial reconoce que el noventa y nueve por ciento de esos accidentes graves y muy graves son evitables y no se están evitando habrá que darle una vuelta a lo que se está haciendo

que por el hecho de que ellos lleven el departamento de trabajo se le instase al gobierno a hacer ese plan

al partido socialista y al partido

vasco por lo tanto nos parece que esa primera parte de nuestra iniciativa era positiva y es

en estos momentos que sabemos que no vamos por el buen camino a la hora de abordar la siniestralidad laboral y en cuanto a la figura

y o sectoriales nosotros desde luego vamos a defender la creación de esta figura y nuestra iniciativa además

nosotros hablamos de acuerdo interprofesional de un acuerdo interprofesional además que en euskadi

el acuerdo interprofesional ha sido firmado por todos los sindicatos falta llenarlo de contenido este podría ser un buen contenido en nuestra opinión

importante que el parlamento instase a que esto se recoja y es una figura que ya existe y desde luego desde mi grupo sí que vamos a defender señora otamendi que esta figura sea una figura sindical lo que no entra en contradicción y yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho usted hacen falta

en osalan relacionados con la prevención en eso estamos de acuerdo y en concreto dirigidos a las pequeñas empresas estamos de acuerdo pero eso no es incompatible con una figura que en mi opinión tiene una importancia grande de que sea una figura sindical porque a veces se nos olvida que los sindicalistas son trabajadores y es muy importante que sean los propios trabajadores los que estén encima de la seguridad y la salud en el trabajo

pero está demostrado que cuando las y los propios trabajadores están encima de esta cuestión la seguridad y la salud en el trabajo es más efectiva por eso a mi grupo sí le parece

que esa figura si así lo tienen a bien acordar sindicatos y patronales tenga un componente de la propia clase

hay delegados de prevención sindicales y creo que ningún grupo defendería que está de más la existencia de esos delegados

que existiese esa figura en las pequeñas empresas pensamos que sería

un importante avance eso sí yo

al que le agradezco el apoyo que su grupo le da a nuestra iniciativa yo creo que los sindicatos

yo soy un convencido de que no se puede defender a los trabajadores sin hacer política también desde el ámbito sindical

la lucha sindical y la lucha política es una misma lucha

asuntos que en ocasiones me dicen diferentes grupos que son asuntos exclusivamente a negociar por patronales y sindicatos yo

pueden tener esa opinión política sobre las cuestiones que afectan al mundo del trabajo y que luego sí nosotros respaldamos que eso

en los acuerdos entre agentes sociales nada más eskerrik asko hernández jauna eh bilduren ordezkaria

bueno evidentemente en mi primera intervención ya he puesto de manifiesto que nosotros no estábamos de acuerdo con la necesidad de elaborar ese plan integral porque el informe anual que se realiza por parte de osalan sobre la siniestralidad laboral ya recoge bastante minucioso diferenciando por sectores de actividad

todos los datos y además incluye la perspectiva de género y además contábamos con el plan de gestión que se elabora de acuerdo con sindicatos patronal

anualmente y por tanto y además contamos con la estrategia vasca de seguridad y salud dos mil quince dos mil veinte y no consideramos necesario la necesidad de tener que realizar además otro plan integral el señor ruiz de arbulo ha señalado que nadie ha hecho referencia a causas y no está equivocado yo precisamente en mi primera intervención

algunas de esas causas que pueden incidir también en la siniestralidad laboral y muchas de esas causas vienen derivadas de esa precarización del mercado laboral que se produjo con la reforma laboral que ustedes introdujeron entonces viene aquí diciendo no sabemos las causas etcétera etcétera sí las causas ya se las he

de esa precarización que se ha sufrido derivada precisamente de la reforma

que ustedes aprobaron y que desde luego es intención del gobierno socialista derogar aunque evidentemente en los nueve meses de gobierno que ha tenido no ha tenido la posibilidad no ha tenido tiempo suficiente para poder

cuando vuelva a formar gobierno después de las elecciones generales y con respecto a la figura del delegado territorial he dejado muy claro que forma parte desde luego tiene que ser aprobada por un acuerdo interprofesional y solamente por autonomía de las partes por acuerdo entre patronal y sindicatos se puede producir puede producirse vía unilateral por el gobierno porque no tendría ninguna validez porque teniendo en cuenta que la legislación y la normativa actual no reconoce ese derecho a las empresas de menos de seis trabajadores sino contáramos con ese acuerdo interprofesional sería inviable porque un empresario que si se crea la figura del delegado territorial por parte simplemente o exclusivamente

vasco y un empresario se le presenta en su centro de trabajo ese delegado territorial desde luego tendría todo el derecho de decirle usted en mi centro de trabajo no entra porque usted no tiene facultades reconocidas no hay ningún acuerdo interprofesional que reconozca su figura y por lo tanto no entra y además la inspección de trabajo no le podría ni sancionar

no está ni tipificado esa situación con lo cual solamente

puede surgir la creación de esa figura del delegado territorial con lo cual no todo el mundo está de acuerdo pero desde luego si existe un acuerdo interprofesional donde se acordara

esa figura tendría plena validez y podría ser

y nosotros considerábamos que donde tiene que tratarse y además es donde se está tratando es dentro de la mesa del diálogo social y esa mesa de diálogo social desde luego están invitados todos

el que no quiere participar en esa mesa de diálogo social lo decide libremente no participar pero la posibilidad lo tiene ahí

ese acuerdo interprofesional donde se recoja esa figura como digo para que tenga una validez y se pueda

aplicación en el ámbito de las empresas es por eso por lo que nosotros defendíamos nuestra enmienda a la totalidad porque lo veíamos que estaba

donde tiene que estar que es en la mesa de diálogo social y por eso defenderemos
nuestra enmienda a la totalidad nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

la necesidad de seguir avanzando en dar pasos en intentar ir reduciendo la siniestralidad laboral y en ese sentido medidas como la que hoy se ha propuesto como la creación

es una cuestión que está ya en el ámbito de la mesa de diálogo social creemos que es el foro

de valorar de analizar y de ver la viabilidad oportunidad de crear estar figura y de darle la forma que se considere por parte de los agentes sindicales necesaria es verdad que en esta mesa están los que están pero bueno cada cual

que se ha reactivado que creo que es un camino adecuado y bueno para tratar cuestiones como esta una figura que efectivamente puede ser puede

a apoyar a estas empresas de menos de seis trabajadores y en este sentido no tenemos ninguna duda

de un plan integral de un plan ambicioso no sé díganme ustedes

tratándose por parte del gobierno hemos detallado someramente todo lo que se hace por parte del gobierno hay herramientas para ello y

duplicar trabajo nos parece a nosotros creo que se dispone por parte del gobierno de la administración de herramientas suficientes

avanzando en lo que nos une a todos en dar pasos para efectivamente

que los datos en relación con los accidentes laborales a nadie o sea a nadie nos gusta a nadie nos gustan a todos nos preocupan

un incremento directamente vinculado en relación con la población trabajadora pero también lo he dicho antes y lo repito porque creo que es importante esta es una cuestión que hay que analizarla

cifras y datos pero es que todos los grupos han hecho referencia a ello y creo que tengo que volver a insistir es importante tener en cuenta que el dato que realmente vale es el índice

el índice se va reduciendo poco a poco es verdad que a un ritmo lento pero

decreciente y esto también es importante aclararlo

siniestralidad y accidente como si fuese sinónimos y no son lo mismo estadísticamente es el índice de incidencia no el número concreto de accidentes laborales y este índice de incidencia

este índice de incidencia el año pasado incluso se redujo un poco si vemos el dato y ese dato en diciembre del año dos mil diecisiete y el mismo mes año dos mil dieciocho

uno por ciento es verdad que es una cifra tímida pero bueno que tiene que ser interpretada como una evidencia de que esta es una tendencia

con esto además no quiero quitar ni un mínimo de importancia a la realidad

ha demostrado hoy y siempre demuestra como hace el gobierno constantemente con su trabajo

garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo garantizar a todas las personas trabajadores un entorno de vida seguro y saludable y en ese sentido el gobierno sigue avanzando y sigue dando pasos siempre nos va a parecer insuficiente siempre nos va a resultar insuficiente siempre que sigan existiendo accidentes laborales evidentemente y sobre todo cuando los resultados son con consecuencias graves pero no les quepa ninguna duda que el gobierno

en un trabajo constante en avanzar en ir reduciendo

y señor arbulo usted ha mostrado ya

ustedes últimamente en apuntarse siempre que es posible

señora otalora no se me haga la víctima que aquí no tratamos de visibilizar que el gobierno no tiene mayoría o que se queda solo en una votación

de los últimos años está creciendo está creciendo y mucho y ustedes dos han bajado aquí a contarnos que ya se está haciendo todo bien que esto es maravilloso y que sigamos así

saben lo que hay en marcha una política inútil que no frena

de fallecimientos de las personas

o yendo a su puesto de trabajo una política inútil que no frena el crecimiento y el incremento de las enfermedades profesionales eso es lo que hay en marcha cuando yo le digo que lo que no se explican son las causas no me refiero a las intervenciones en la tribuna de la señora sánchez

no vengo aquí a que me cuente su discurso político que todo se debe a la reforma laboral que nos sirvió para crear empleo que ahora se está destruyendo y veremos

lo que me refiero es simplemente a que los informes de osalan lo que no tienen es una previsión de las causas o de corrección de los motivos y las causas de cómo año a año

esas son las causas que faltan no la causa de por qué ustedes no quieren votar la iniciativa de elkarrekin podemos no la causa de por qué ustedes quieren que solamente los delegados se creen dentro de la mesa de diálogo social no fuera de la mesa de diálogo social no ahí no queremos no queremos los delegados

se hagan en esa mesa pero qué les preocupa a ustedes qué la mesa funcione o que los accidentes de trabajo disminuyan porque igual hay otros agentes sociales representantes de determinados ámbitos profesionales que sí pueden ponerse de acuerdo

y la protección de los trabajadores que creo que es realmente lo importante porque aunque el señor hernández me diga que no

y no es el interés fundamental la protección del trabajador o de la persona que busca trabajo lo hemos visto en los últimos años cómo evoluciona

y lo que hace falta es huelga y conflicto eso lo hemos leído en los periódicos estos días no no hace falta huelga y conflicto lo que hace falta es que haya más

eso es lo que necesitamos este país no necesita huelga y conflicto que bastante hemos tenido apoyado o sustentado por sindicatos con intereses espurios
no obstante voy a apoyar su iniciativa muchas gracias eskerrik asko

ehuneko hogeita hamabostaren inguruan dago y con todos estos datos macroeconómicos tan positivos qué hace euskal herria bildu proponiendo una ponencia de trabajo se preguntarán algunos y la respuesta es lo que nos dice el sector la incertidumbre

momentos de incertidumbre clara desde las amenazas de recesión generales hasta el papel de los países asiáticos el sector está ante un punto de inflexión

la conducción conectada y automatizada los retos ambientales los cambios sociales y una creciente globalización

nosotras defendemos la mano visible de una política industrial que tenga como objetivo generar y repartir

una mano visible que impulse el desarrollo tecnológico ambicioso a la par que realista una mano visible que ayude en los cambios estructurales que debe acometer el sector en su cadena de valor

cómo vamos a crear nuevos empleos en nuevos campos frente a los que ya se prevén que van a desaparecer y cómo vamos a modificar

cómo vamos a hacerlo los procesos de manufactura tradicionales se van a transformar estamos en esa revolución tenemos que incorporar la robótica la inteligencia artificial el almacenamiento de energía la electrificación y la bioeconomía

tenemos un montón de retos tenemos los cambios en los hábitos de consumo dos tendencias muy claras por una parte la servitización y por otra la personalización los análisis que tenemos delante nos hablan de que nos dirigimos a dos tipos de productos muy diferenciados en el automóvil por una parte los cambios de hábitos nos llevan a una servitización

menos interés en ser dueña de un coche pero quiere el servicio que este supone

que necesitemos y en el lugar donde estemos avisaremos y querremos tener un coche

ese tipo de coches que vienen serán vehículos completamente estandarizados intercambiables muy simples

esta es una parte pero por otra tenemos un sector también

que quieren no renunciar a una conducción esto nos lleva también a grandes cambios en las plantas de producción tendremos cambios que suponen que los que produzcan coches básicos e idénticos

y las previsiones actuales es que para europa eso supondrá al menos un treinta por ciento

estas plantas introducirán en mayor medida todavía la automatización

y tenemos el otro tipo de planta que necesitaremos donde se tendrá que trabajar absolutamente a la carta para lo que quiere el cliente totalmente flexible un segmento sin ninguna duda también mucho más caro todo esto nos va a cambiar el modelo de negocio evidentemente pero también el modelo de negocio de los concesionarios cómo se va a hacer a partir de ahora la venta de coches

y por otro lado también tendremos las compras online que irán al alza

también tenemos el reto de la digitalización los coches han ido incorporando cada vez más computación tenemos control de frenos control de puertas control de cinturones de seguridad reguladores de velocidad gps la electrónica dentro del vehículo no es ninguna novedad

por una parte desde luego para aumentar los estándares de seguridad y por otra también para que la propia conducción sea cada vez más agradable más sencilla esta digitalización

y eso también supone que los conocimientos de ingeniería informática cada vez van a tener más peso

la conectividad y la automatización de estos vehículos tendremos sensores internos que transferirán información

y con las infraestructuras para dar y obtener información la velocidad de transformación desde luego también va a ser diferente por segmento de vehículos pero pensemos lo que supone esto

las carreteras deberán de empezar a tener sensores que debemos equipar para transmitir estas informaciones y para garantizar toda esta conectividad de lo que estamos hablando es del bostg

con lo cual también nos preguntamos cómo puede en un momento como este nuestro banco semipúblico kutxabank vender acciones de euskaltel

cómo pretendemos hacerlo nos vamos a hacer estas preguntas en serio

y cómo afecta además todo esto a los suministradores de componentes desde luego

es muy relevante el tipo de empresas que tenemos y es posible que pueda aumentar este valor añadido eso supone que se va a desplazar también hacia la parte electrónica que en estos momentos viene a ser un tercio de ese valor pero el desplazamiento se prevé que sea en ese sentido

inprimatzaileak ere enpleguan eragingo dute vamos a hacer una propuesta de estrategia conjunta en este sentido

tenemos variaciones también en materias primas uno de los objetivos fundamentales

el uso de nuevos materiales también lleva alineadas nuevos cambios en la forma de producir plásticos aluminios todos han demostrado su utilidad también en el automóvil

se introducirán nuevos materiales y estamos pensando en metales raros para baterías eta kotxea dugula beti tailerretara eraman beharko dugu momenturen batean

eta tailerretan ere beharko den kualifikazio eta ezagutza aldatzera doa lo cual nos lleva también a otra cuestión clave

el tema de la neutralidad tecnológica vamos a avanzar en ese sentido vamos a abandonar apriorismos para analizar tecnologías incluyendo las que no están maduras claro

de personas en cadenas de montaje y los cambios que se van a producir de la reducción de empleo en estas áreas las empresas de utillaje y los cambios en las materias primas hablamos de cambios

las app para utilizar los coches los servicios que se desarrollaran asociados a los concesionarios los y las trabajadoras

la necesidad de dotar de más ingeniería a los componentes auxiliares los cambios en las infraestructuras de transporte

la electrificación la variación de combustibles las necesidades de formación permanente

y la pregunta es seguiremos escuchando el tiempo en la radio y el estado de las carreteras

seremos meros usuarios de los coches y hablaremos en esos términos o vamos a ser protagonistas en el mundo de la automoción nosotros creemos que hay que ser protagonistas de ese futuro no queremos que otros tomen las decisiones por nosotras sino que queremos una política industrial proactiva y consensuada horregatik

el sector de la automoción pide pactar la transición eléctrica eraldaketa sakonak

al káiser guillermo segundo cuando le enseñaron el primer vehículo el primer coche

el coche es un fenómeno temporal yo creo en el caballo esta afirmación que ha pasado a la historia como un ejemplo de cómo un

en la realidad podría aplicarse perfectamente a lo que empieza a suceder a lo que está sucediendo con

europea del automóvil preferimos lo que tenemos

europea del automóvil tienen que ver con el producto que están fabricando ahora mismo con el qué y otros tienen que ver con el cómo

como otros son en cualquier caso retos inevitables retos que no

digamos son críticos con el automóvil son retos que está poniendo la evolución de la sociedad la evolución humana a día de hoy a día de hoy

se están vendiendo cien millónes de vehículos en el mundo pero no se dice que se están fabricando cada año

de vehículos de los que se venden es decir a día de hoy ya existe una sobrecapacidad global

estén en regímenes de producción del treinta del cuarenta o del cincuenta por ciento de su capacidad real en plena crisis en el año dos mil once

a un diez por ciento de su capacidad y aun así se producen uno millón más de vehículos de los que se venden en el mundo por lo tanto hay unos retos inevitables

es afrontar lo que ya en la industria petroquímica que va un poco por delante se ha llamado el síndrome de la sabana

refinerías en europa las refinerías de petróleo son como una manada de cebras que avanzan por la sabana y su objetivo a día de hoy ya no es

las primeras sino no ser las últimas porque a la última se la come el león y ese es el reto al que se van a enfrentar al que se van a empezar a enfrentar muchas plantas de producción de automóviles en europa lo mismo que ya está sucediendo con muchas refinerías de petróleo llevamos ya más de treinta refinerías de petróleo cerradas en europa eso es una realidad que nos viene queramos o no lo ha dicho la señora larrión

exijitzea eta dena ematea industriari el papel de las instituciones las instituciones europeas españolas o vascas ha sido a día de hoy el de cuidar la gallina de los huevos de oro porque efectivamente la industria de la automoción

que nos ha dado y nos da riqueza ha sido una industria que nos ha dado y nos da empleo de calidad y ha sido una industria que nos da nos ha dado y nos da y esperemos que nos siga dando impuestos que permiten financiar otros servicios

pero las instituciones no le han pedido nada a la industria en europa han hecho la vista gorda

motores les han dado todo lo que han pedido a base de planes pive y planes renove para renovar las flotas europeas y esto ha provocado la complacencia la autocomplacencia de una buena parte de la industria

a la complacencia y la complacencia lleva al fracaso y en esa tesitura nos encontramos a día de hoy la encrucijada a la que se enfrenta ahora mismo la industria europea del automóvil es que tiene que

para mantener el negocio y me estoy refiriendo a la industria cuatro punto cero que tienen que hacer frente a un producto madura con una capacidad de innovar relativamente pequeña y me refiero a los motores tanto los diesel como los de gasolina y que tiene que hacer frente a competidores muchos más flexibles que ponen

tanto el modelo de negocio y me refiero a las redes de concesionarios como el modelo organizativo y de toma de decisiones que ahora mismo tienen las plantas europeas de automóviles siempre centralizadas en la base principal y la cuestión la cuestión es

tanto los fabricantes como las instituciones a esta

porque las alternativas son muy simples los fabricantes o se adaptan evolucionan e innovan o esperan a sufrir

y tengamos en cuenta que no solamente estamos hablando y ya lo ha dicho también las señora larrión de las fábricas de montaje en euskadi en mercedes benz trabajan cinco mil trabajadores y trabajadoras

por lo tanto el reto no se ciñe exclusivamente a los fabricantes de automóviles sino también de componentes y hasta ahora

una parte de esos fabricantes por no decir todos se han dedicado a condicionar las políticas públicas las políticas públicas en el sentido de pretender que todo siguiera igual y esto es un empeño vano mejor hubieran hecho en condicionar las políticas públicas para adaptarse y liderar el cambio en efecto adaptar y liderar el cambio es un camino incierto esperar que todo siga igual es el fracaso seguro y eso nos interpela también al papel que deberán adoptar las instituciones

tapia que no está hoy sobre el plan renove sobre el objetivo que tenía el plan renove que ha puesto el gobierno vasco recientemente en marcha ese plan

entre el ochenta y cinco por ciento y el noventa de su producción y tampoco ayuda

en dos mil catorce se hizo un análisis de a que vehículos se había ayudado el plan pive que había puesto el gobierno de españa en marcha

era un vehículo fabricado en rumania y el tercero más vendido estaba fabricado en francia de los cuarenta y cuatro mil vehículos que se apoyaron con el plan renove

producidos y ensamblados y montados fuera de españa es decir los planes pive y renove no sirven para

es falso es dinero mal gastado es una orientación errónea de las políticas públicas

la reflexión necesaria porque no se ha analizado realmente hacia dónde tenemos que ir ese análisis se puede hacer como ha dicho la señora larrión

en alemania por cierto donde quienes están en el gobierno son los verdes

y ese análisis se ha hecho con un diálogo sincero y con una colaboración entre las plantillas los fabricantes y las instituciones y eso es lo que tenemos que traer aquí y en eso coincido con la señora larrión

a qué hacer para adaptarnos al cambio y no a qué hacer para quedarnos donde estamos eta erantzunak etorriko dira berrikuntzatik

eskutik eta eragin sozialaren eskutik tenemos que buscar la innovación la sostenibilidad y el impacto el valor social

tenemos que buscar vehículos más eficientes y funcionales tenemos que buscar una producción más flexible y avanzada tenemos que buscar una economía circular real que le dé a la industria del automóvil el acero el aluminio

y los materiales que necesita para hacer las baterías pero señoras y señores y con esto voy terminando en euskadi

dando palos de ciego como ha sido el plan renove no podemos hacerlo porque nos estamos jugando mucho gobernar es liderar la transición y los cambios no al dictado de la industria sino con la industria

a elegir el rumbo adecuado y gobernar es planificar el futuro y la transición

es un riesgo que no nos podemos permitir porque como digo nos jugamos mucho gracias eskerrik asko becerra jauna zuzenketako aurkeztu

estamos inmersos en una desaceleración económica esoestá encima de la mesa de todos los analistas en estos momentos analistas económicos

el sector entra en recesión por primera vez desde dos mil trece principalmente por la caída de exportaciones y por el impacto de las normas de emisiones en la automoción

son inquietantes el pasado septiembre inició una tendencia a la baja

a hundirse un cinco coma nueve por ciento en el último mes de dos mil dieciocho diciembre de dos mil dieciocho este

en plena recesión económico y cuando españa estaba a punto de ser

es cierto que la producción industrial está cayendo en todo europa pero es que en españa a más del doble las fábricas pierden empleo por primera vez desde dos mil doce

fue el único sector que destruyó puestos de trabajo en dos mil dieciocho

en muchas plantas de producción las fábricas españolas de automoción en enero daban

un uno coma cuatro por ciento menos de unidades colocadas en el mercado que el año anterior y las exportaciones cayeron un dos coma siete por ciento

es de las más relevantes en manufactura la acción del gobierno de sánchez la guerra contra el diesel ha puesto la puntilla

y está teniendo efectos muy dañinos hay que tener en cuenta que las manufacturas y la industria tienen un efecto arrastre en otros sectores incluido el de servicios

muy importante en el país vasco el sector de componentes de automoción es de los más innovadores y competitivos sus niveles de gestión son los más avanzados del mundo con un alto grado de eficacia y eficiencia más de trescientos empresas que facturan en torno a dieciocho mil millónes empleo

la facturación del sector de automoción representa el veinticinco por ciento del pib vasco y casi un cincuenta por ciento del total del sector de componentes de automoción en españa

se generan fuera de españa se han incorporado nuevas fábricas en el extranjero doscientos ochenta y cuatro plantas productivas en veintinueve países tanto en mercados emergentes como en mercados tradicionales contamos en el país vasco con un centro único de generación de valor para el sector de automoción el aic

la formación la tecnología y el desarrollo competitivo en sus instalaciones trabajan

de novecientos cincuenta personas hace un mes celebraba sus diez años de actividad además el país vasco cuenta con cuarenta y ocho multinacionales del sector con importantes centros de competencia que aportan valor al conjunto de la industria

tenemos ochenta fabricantes de máquina herramienta setenta mecanizadores además de matriceros fabricantes de bienes de equipo centros de formación cuatro universidades y once centros tecnológicos el setenta por ciento de las empresas de automoción

noventa por ciento están certificadas por un referencial del sector iso setenta y seis barra dieciséis mil novecientos cuarenta y nueve

señorías esto tan importante está en el aire efectivamente el sector de la automoción se enfrenta a retos importantes

estamos en un punto de inflexión histórico el vehículo conectado efectivamente un mundo de incógnitas para resolver y recorrer el camino a llegar al vehículo autónomo muchísimas cosas que desconocemos cómo se van a resolver la reducción de emisiones el cumplimiento de la normativa europea está haciendo saltar muchas alarmas es así en este tema en la comparecencia de representantes sindicales

se hacían preguntas preguntas que ellos que están en el sector

decían que nos estamos centrando en el verdadero problema y demostraban con datos

que las emisiones ce o dos dependen más del modelo concreto del vehículo

la mitad de las partículas en el aire proceden de frenos de embragues y neumáticos tenemos legislación que regule las emisiones de desgaste mecánico por qué miramos para otro lado en este asunto por qué no es también motivo de cuestión y se preguntaban además cuál va a ser el motor del futuro va a ser eléctrico va a ser de combustión va a ser el de explosión

señorías hay incógnitas muchas la actual infraestructura eléctrica es insuficiente en motor en cargadores en tiempo de carga tres horas de carga para cincuenta kilómetros doce horas de conexión para carga total y cómo afecta esto al empleo el empleo y el impacto laboral que esto tiene

en la reducción de emisiones y advierte del impacto que tendrá en la amortización de empleos en el sector el sindicato

publicaron de forma conjunta un estudio en el que se advertía que solo en alemania el salto

pero es que en diciembre del dos mil dieciocho ford comunica el cierre de su planta de burdeos despide ochocientos cincuenta trabajadores también ford comienza el ajuste en europa de supresión de dos modelos mil seiscientos trabajadores despedidos en alemania volkswagen eliminará un tercio de los empleos en hanover y emden siete mil de los veintidós existentes

auxilio político la planta está en un cuarenta por ciento de producción tesla

despedirá tres mil doscientos empleados para rentabilizar

las acciones de la compañía han caído un trece por ciento mercedes

y estamos orgullosos de ellas y nos da muchas oportunidades de desarrollo económico y de formación y de empleo

se destruyeron ochocientos puestos de trabajo si aplicamos

el mayoritario del sector del metal en alemania con el vehículo eléctrico en mercedes de cinco mil empleos directos pasaríamos a tres mil setecientos cincuenta

es decir un empleo se perdería por cada cuatro se destruyen cinco mil puestos de trabajo amortizados sería el resumen en álava con

señorías tendremos que fijar como prioritario el mantenimiento del empleo es fundamental si no a dónde vamos y habrá que ver cómo adaptamos la legislación en qué tiempos la adaptamos pero priorizando el mantenimiento del empleo y la actividad

si no no vamos a cumplir algo que se está diciendo constantemente no podemos dejar a nadie tirado en el camino eso es destrucción de la sociedad por lo tanto

vengan al parlamento vasco ayer mismo registramos la comparecencia de

en esta cámara y también teníamos una lista de posibles representantes en esta cámara de la automoción eh bildu en su iniciativa

analizar el futuro del sector de la automoción como bien se ha explicado aquí la señora larrion la realidad casi general de las ponencias de esta cámara

en muchos casos no referentes a proyectos de ley es bastante

no hay argumentos a veces hay argumentos a veces no no sabemos por qué no se hace determinados informes se paraliza la ponencia

y es una falta total de respeto para aquellos ponentes que participan y no cuentan luego con un informe de la ponencia

respondido que sí a esa invitación a participar en una ponencia por eso lo he dicho muchas veces

no nos gustan nos sirven para autoanestesiarnos para dedicarle un tiempo opaco porque como digo en aquellos casos en que sale

hemos hecho informe nuestro voto inicial a la ponencia clásica propuesta por eh bildu no nos gustaba y de hecho

pero la enmienda de transacción que nos plantean de una ponencia

que cambia lo vital nos satisface y podemos votarla a favor y de hecho vamos a votarla a favor no es cuestión de si el gobierno gana o pierde una votación la cuestión es de si el sector de la automoción es lo suficientemente importante para que participe en una ponencia abierta

y por eso nuestro voto va a ser favorable a la enmienda de transacción que se ha presentado

señora larrion los socialistas vascos hemos analizado

cómo se está enfocando el futuro del sector vasco de automoción en lo que a las instituciones públicas les afecta y hemos relacionado también el planteamiento de esa enmienda transaccional que planteaban ustedes con elkarrekin podemos

que hemos debatido y hemos aprobado también en el pleno de esta cámara y creemos que su iniciativa que la enmienda transada no aporta un plus o un extra a los requerimientos que ya se han hecho a las instituciones públicas y al trabajo

el gobierno respecto al sector de la automoción más allá de solicitar como dice su enmienda la anticipación del sector a las regulaciones europeas

en el liderazgo que tanto el gobierno de españa como el gobierno vasco están manteniendo para que el sector de la automoción pueda afrontar de forma planificada de forma ordenada y coordinada

ecológica que está ya en marcha un liderazgo con acciones consensuadas con el sector como por ejemplo el plan estratégico de apoyo integral al sector de automoción que acaba de aprobar el gobierno de españa los planes moves los planes renove que se están también poniendo en marcha y que empezarán su actuación práctica

debemos tener en cuenta la iniciativa que aprobamos en este parlamento el pasado mes de octubre de dos mil dieciocho sobre el impuesto al diesel entonces debatíamos

y su afección estrecha y directa con el sector de la automoción en el que se ponían deberes para el gobierno vasco y en tercer lugar no podemos pasar por alto

por un lado la ley de sostenibilidad energética vasca y la proposición no de ley transada por una amplísima mayoría del parlamento vasco respecto al pacto vasco

debatimos ese catorce de marzo este tema en el que se recogía además de un análisis una parte resolutiva expresa

muy prácticas para llevar a cabo en ese pacto vasco de la energía y los socialistas vascos lo que tenemos muy claro es que el peso del sector de la automoción en la economía la relación que mantienen los gobiernos tanto de españa como de euskadi con el sector

en europa en españa y en euskadi tiene y tendrá que ver

y de manera sustancial con el futuro energético de europa de españa y de euskadi y partimos del hecho de que el sector de la automoción es uno de los principales motores de la economía europea porque representa el seis por ciento del producto interior bruto

de trabajos en europa eso supone un cinco coma tres por ciento del total de trabajadores por tanto es verdad estamos ante un sector de gran importancia y por ello a los gobiernos vasco y español no les resulta ajena del sector de la automoción el gobierno de pedro sánchez ha mantenido una interlocución directa con el sector de la automoción para llegar a ese plan estratégico de apoyo integral al sector de la automoción que se aprobó este mismo mes de marzo un plan que se justifica en su parte expositiva

a los que se enfrenta el sector de la automoción el impacto de la digitalización

y hasta los cambios recientes en los modelos de negocio del sector

y un modelo económico más circular y como tercer reto está la globalización y la competencia

a innovar a renovarse y a aprovechar su potencial para ocupar una posición relevante entre los líderes europeos y mundiales en españa el sector de la automoción supone trescientos mil empleos directos y más de dos millónes de empleos indirectos

se exportan y nuestros competidores en este sector y los países a los que exportamos están marcando un plazo para prohibir los coches de combustión en torno

para el desarrollo presente y futuro de la industria vasca en euskadi el sector está representando por el clúster acicae que a lo largo de la pasada crisis estableció una estrategia

la viabilidad de todo tipo de empresas afectadas

los objetivos del clúster de la automoción de euskadi son mejorar la visión estratégica del sector de la automoción fomentar la cooperación entre las empresas socias en distintas materias facilitar

y obtener sin duda alguna más clientes impulsando la formación y la adopción de nuevos modelos avanzados de gestión

estatales y europeos que aporten valor al sector lo decía antes la señora

el sector vasco de componentes de automoción es uno de los más competitivos e innovadores que factura

en el país vasco que dispone de una presencia internacional y que cuenta con cuarenta y ocho multinacionales del sector con importantes centros de competencia que además aportan

con un porcentaje de facturación medio destinados a estas actividades del cinco por ciento y hay más de tres mil personas dedicadas a estas labores

que un sector tan globalizado es vulnerable también a los acontecimientos de los mercados internacionales pero también esa misma globalización puede ser su principal fortaleza para superar dificultades compartimos los socialistas vascos con el gobierno su valoración de que la automoción atraviesa un momento extraordinario y que necesita

en españa en euskadi y con el conjunto de europa el gobierno está trabajando además junto con el sector en varios frentes en euskadi participando en la nueva estrategia de aceleración de compatibilidad en la que se destaca la electrificación de los vehículos en sus distintos niveles sin olvidar otros sistemas como el gas y el hidrogeno

y dando una oportunidad a la neutralidad tecnológica en bruselas la delegación del gobierno vasco ha propuesto activar el grupo de regiones líderes en automoción cuyo objetivo es influir ante la comisión europea para que adopte medidas que contribuyan a fortalecer del sector europeo la automoción en euskadi ha sido y es líder tecnológico y se está preparando para responder a esos retos pero necesita tanto en europa como en españa y en euskadi una máxima definición de la estrategia futura en segundo lugar otro de los motivos para no apoyar su iniciativa es el debate y el acuerdo al que llegamos en octubre del años pasado sobre

porque aprobamos en aquel entonces hace unos meses por amplio consenso una enmienda en la que además de mostrar nuestra preocupación por la incidencia que la delicada situación que atraviesan algunos segmentos del sector de la automoción

instábamos a los distintos agentes públicos y privados a actuar con responsabilidad para evitar efectos negativos sobre la industria y el empleo en euskadi y en concreto

a adoptar medidas que ayuden a evolucionar el sector de la automoción y al mantenimiento del empleo entre ellas los planes de renovación y otras medidas para acelerar la introducción de vehículos con combustibles alternativos poniendo en marcha para ello acciones que logren vencer las barreras y la reticencia al cambio algo que

pues era uno de los acuerdos a los que llegamos el pasado dieciocho de octubre

ante el nuevo paradigma de la movilidad en ciernes a que continuase profundizando en el proceso de reflexión dirigido a identificar los retos oportunidades amenazas y debilidades

con la movilidad en general y la automoción en particular y esas conclusiones de esa reflexión serían la base de la planificación estratégica

y la actividad productiva lo decíamos y lo aprobamos nosotros y nosotras y en marzo debatimos los parlamentarios y parlamentarias sobre el pacto vasco de la energía y llegamos a un amplísimo acuerdo en un texto transado por todos los grupos políticos menos el partido popular que se abstuvo

ni exento de compromiso político y de gestión y también emplazaba a cómo crear la comisión de expertos a qué se tenían que dedicar esa comisión de personas expertas

para dos mil treinta específicamente con trabajos también sobre la industria y el sector de la automoción bien

para llegar a ser neutros en emisiones de carbono en dos mil cincuenta

en el texto principal de esa comisión o bien en forma de anexos por lo tanto también tenemos la ley de sostenibilidad energética de euskadi en la que hace una especial referencia

sostenible con compromisos concretos y específicos por tanto ya hay iniciativas en marcha ya hay iniciativas acordadas hay un liderazgo de los gobiernos tanto de españa como del gobierno vasco y por lo tanto entendemos que esa ponencia que ustedes nos la ofrecen para

entendemos que no aportan ningún plus a los trabajos que ya están encargados y encomendados tanto al gobierno vasco como a este parlamento nada más y muchas gracias eskerrik asko

las conversaciones y los compromisos adquiridos en esta cámara realmente como eso tiene más que ver con la ética y hemos venido hablar de automoción voy a hablar de automoción y empecemos por lo principal el sector del automóvil en euskadi sector estratégico hoy está desde el punto de vista tecnológico posicionado como referente y vanguardia en europa

y a esta situación actual se ha llegado tras haber sufrido en dos mil ocho una importante crisis

el clúster que reúne a la totalidad del sector en esos años se diseñaron medidas para mejorar la capacidad productiva de las empresas las competencias profesionales ayudar a la readaptación de las mismas internacional el sector y sobre todo fomentar la modernización de procesos y productos a través de más i primera conclusión si acicae

también parece posible y así lo entendemos en nuestro grupo que puedan salir de la crisis que pueda venir derivada de nuevos problemas sin necesitar de ayudas ni siquiera la de este parlamento a pesar de todo y aunque la automoción está travesando un buen momento eso no quita y ya se ha dicho aquí se ha hablado

que haya que continuar efectuando una máxima definición de su futura estrategia por cierto no solo en euskadi

pues interactuamos permanentemente y dependemos de decisiones y estrategias de muy diferentes ámbitos y es que hay que darle vueltas a diferentes tipos de circunstancias que siguen enredando y complejizando el futuro a un sector global que es fundamental para euskadi tanto por empleo como por riqueza generado por ejemplo podemos pensar en la crisis del diesel o si ciertas declaraciones con que algunos autoridades

son más o menos frívolas y ponen en el disparadero al sector coyuntural o estructuralmente o si el cierre de las ciudades al tráfico automovilístico y la promoción de nuevos sistemas de movilidad

provoca y o provocará descensos coyunturales o estructurales en la producción de las empresas automovilística con los consiguientes pérdidas de empleo y de riqueza en general y todo eso

las capacidades tecnológico industriales la demanda de los consumidores del futuro en todo el mundo

de las relaciones comerciales que hay entre estados unidos y europa en estos momentos y todo ello ha generado un ambiente que realmente es complejo y que hay que ir superando y en ese sentido

conjuntamente con el gobierno ya llevan tiempo trabajando en la nueva estrategia de aceleración de la competitividad en la que se destaca sobre todo todos los proyectos

para ir conjuntamente a debatir a nivel europeo que es

ha activado el grupo de regiones líderes en automoción con el objeto de influir ante la comisión para que se adopten medidas que contribuyan a fortalecer el sector europeo

y ya se ha superado hay problemas y se está trabajando para ir superándolos todo ello en conjunción entre el gobierno y acicae es decir entre la administración

no mejorarán necesariamente porque se cree una ponencia en el parlamento vasco y esa es la segunda conclusión

que son quienes de verdad saben analizar el problema y sus posibles soluciones desde la perspectiva que realmente tiene además de que nada solucionaremos

unos problemas que también ya lo he dicho exceden muy allá de las fronteras de nuestro país la ponencia solo sería un foro más que tarde o temprano y creo más lo segundo que lo primero terminaría por intentar enredar el trabajo serio que ya se viene haciendo además dice el reglamento de esta cámara en su artículo cincuenta y uno punto cinco que

así como para realizar el seguimiento de asuntos de interés estas ponencias estarán compuestas por un representante de cada grupo parlamentario la propuesta original de eh bildu

la ponencia parlamentaria con las personas representantes de los trabajadores y las trabajadoras oyendo las aportaciones de las empresas y las personas expertas del sector etcétera bien se utiliza muchas veces el argumento de que la traducción no está bien hecha

a ver si la ponencia la tienen que conformar los parlamentarios pues que se proponga eso

gestores de empresas del sector usuarios representantes públicos el arzobispo de calahorra quien tenga que venir pues eso es algo que tendrá que determinar la ponencia una vez conformada lo que yo nunca había visto era una ponencia en la que destaque

están los representantes de las y los trabajadores y luego ya si eso pueden venir algunos expertos y hombre esa redacción reconózcame no animaba mucho a aceptar

es formalmente una ponencia por proponer ponencias que no quede

como se ha hecho como oportunidad electoral aprovechando que además la empresa más grande automovilística está aquí en gasteiz y la que propone es candidata a gasteiz o

esos aspectos no están previstos en el reglamento del parlamento vasco para conformar una ponencia

lo que obliga adaptaciones continuas la actual posible crisis viene derivada básicamente del paulatino abandono de los combustibles fósiles como pura supervivencia del mundo

última y más relevante motivación para no aprobar su propuesta

el nuevo cambio profundo que se va a producir que ya se está produciendo es el de modificar motores de combustión por motores eléctricos y eso realmente no es un cambio es una revolución

cuándo tendremos suficientes electrolineras cuándo se producirán motores con suficiente autonomía etcétera aspectos todos ellos y muchos más

prepare sus adaptaciones calcule costos y calendarios para sus modificaciones aspectos que por cierto ninguno de ellos resolveremos en la ponencia que podamos conformar en este parlamento en el debate de hoy en cualquier caso me interesa resaltar que esa gran modificación

y gastar energía es decir entra de lleno absolutamente en la formulación del pacto de la energía suscrito hace solo dos semanas

habla de hoja de ruta para que la economía vasca llegue a emisiones de carbono neutras habla de que el grupo de trabajo que se cree incluirá un análisis sobre movilidad habla de que la transición energética traerá cambios en el tejido productivo

que trabaje para que esa transición esté coordinada con la política industrial exactamente

que haga la ponencia es decir la problemática de la automoción está directamente ligada al proceso de transición energética y por tanto al pacto firmado no parece pues oportuno

por un lado nos piden ayuda para crear y sostener puentes por el otro

u otros puentes si ustedes se rieron del plan renove del gobierno vasco

les parecía fenomenal y que esa era la vía para ayudar a la industria y a los trabajadores al tiempo de ver que ese plan según

a quedar bien creando esta ponencia conjuntamente con los trabajadores porque queriendo salir de un embrollo están entrando en el de cargarse un pacto recientemente suscrito que no contempla para nada la creación de ponencias para tratar parcialmente asuntos subordinados de la transición energética los puentes llevan muchas vías y no se pueden abrir unas y explosionar otras el puente es un conjunto en armonía

tienen que ser robustos y seguros pero mire a ver si van aprendiendo a hacer puentes y a sostenerlos ustedes

puentes sabe que vamos a tener también que equipar los puentes con tecnología bostg y que vamos a tener que equipar también con diferentes

no precisamente para hacer otro tipo de alegoría sino para hablar de realidades y de futuros

diría que me ha sorprendido señor tellería cuando ha hecho la referencia a

muy buenas y supondría un reconocimiento a que la propuesta es muy bueno pero le iba a hacer casi un chiste de que

la noticia de que se va a crear una ponencia para trabajar sobre algo y todos sabemos

que se creen grupos de trabajo para anunciar algo pero sabe cuál sí sería algo para que

que este gobierno decidiera no enfrentarse otra vez al parlamento y decidiera trabajar con el parlamento eso

llevan ustedes muchos meses decidiendo enfrentarse sistemáticamente contra este parlamento vivimos en un sistema parlamentario no presidencialista

con el parlamento no contra el parlamento creo que ustedes otra vez los grupos que sustentan al gobierno han decidido ir contra

trabajar a favor de algo creo que eso es trabajar a futuro

al pacto de la energía que efectivamente también propusimos

sin ninguna duda también avanzar y creo que todos estaremos de acuerdo en que donde tengamos los puntos de intersección entre la ponencia de automoción y la ponencia de energía no trabajaremos doblemente

de automoción para no tener que duplicar los trabajos y creo que eso se arreglará de forma bastante sencilla

donde esta es la forma habitual de trabajar lo mismo que en toda europa el diálogo social se establece con absolutamente todos los agentes y no se trata

de forma unilateral entre gobiernos y empresas al revés todo lo contrario las políticas precisamente más avanzadas en europa van en la dirección contraria y se abren los diálogos y los espacios de trabajo absolutamente a todos los agentes

de los trabajadores pero además como ustedes decían ustedes establecen únicamente gobierno y empresas y dónde dejan a la academia y dónde dejan

tienen mucho que decir nos preocupa mucho y se lo hemos referido casi todos el potencial pérdida de trabajo que va a suponer los cambios en la automoción por eso es tan importante crear esta ponencia y además por otra cuestión cuando se dice que acicae es suficiente

un agente fundamental pero para plantear el futuro de nuevas empresas nuevos sectores para trabajar y para que los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo puedan hacerlo

creo que esa nos corresponde absolutamente a todos y ese sería el liderazgo de una política industrial donde no pone todo el peso precisamente en las empresas que existen sino que

un liderazgo que suponga hablar de empleo hablar de innovación

en estos momentos no lo décimos solo nosotros

que es suficiente lo que está haciendo el gobierno con las empresas bueno

no decían no nos interesa hablar con el resto de partidos todo lo contrario nos han planteado que es un trabajo conjunto para todos y nos solicitaban absolutamente todos que teníamos que trabajar con ellos con lo cual empecemos a escuchar a los representantes de los sectores que cuando nos reunimos con ellos no afirman exactamente lo mismo que dicen aquí

que acordemos qué nos piden a todos que nos involucremos qué nos piden a todos que reconozcamos la realidad que tenemos delante qué nos piden a todos pues que efectivamente hagamos lo que nos corresponde hacer desde las responsabilidades que nos confieren las personas que confían en nosotros

es lo que planteamos aquí una excelente oportunidad donde efectivamente el trabajo que esté desarrollando todo el mundo incluyendo

que se les ofrecerá la oportunidad de que nos cuenten en esa ponencia todo lo que están desarrollando donde los diferentes

representantes nos puedan hablar de todos los sectores que no va a ser únicamente industria que va a ser también conocimiento y que pueda ser hasta tal y como se decía efectivamente salud

que tendrán que comparecer no serán los únicos que pueden aportar y desde luego serán importantes pero la cuestión es trascender las limitaciones que nos quieren imponer ir bastante más allí

no cumplía los esquemas cerrados que nos plantean aquí los partidos que sustentan al gobierno

más ambicioso socialmente más ambicioso en objetivos creo es lo que vamos a sacar hoy aquí y desde luego cuando se inicie la ponencia esperemos que más allá de la cerrazón inicial que tienen de no participar podamos contribuir todos incluyendo les invito a los dos partidos que sustentan al gobierno también a hacer
aportaciones en positivo que creo que es lo que de verdad se nos exige eskerrik asko

que estemos hablando de la creación de una ponencia parlamentaria que va a ser apoyada por grupos

seguramente la señora lópez de ocariz y yo no vamos a coincidir en nada

la crisis del diesel pero sí estamos de acuerdo en crear una ponencia sobre un asunto de indudable interés para escuchar a quienes sí saben y que de ahí salga un informe que pueda ayudar al gobierno vasco y al resto de instituciones vascas a tomar las decisiones que importan y yo creo que eso es fundamental

la señora lópez de ocariz y yo podremos debatir

sobre si para impulsar el vehículo eléctrico hay que acabar o no con el diesel y viceversa

son complementarios y además el futuro es indudable que es del vehículo eléctrico el asunto es cómo hacemos esa transición

vehículos diesel o de gasolina tenemos que en lo que va de año y solo llevamos tres meses el precio de la gasolina se ha incrementado un ocho por ciento y el del diesel casi un diez por ciento es decir que posiblemente lo que está provocando que no se vendan vehículos diesel y de gasolina ya no es la ministra para la transición ecológica

sino que el combustible barato empieza a ser historia

en dos mil seis a puertas de la gran recesión de dos mil ocho quizás si empezamos a valorar esas cuestiones entonces tendríamos que analizar

para el plan renove si no hubieran sido más efectivos aplicados en otras políticas como por ejemplo en políticas para el desarrollo de las baterías eléctricas

europea para desarrollar los vehículos eléctricos sí coincido con el señor tellería en que el futuro de la industria del automóvil el futuro de las ventas no es solamente

una multiplicidad de factores entre las cuales no es menor el hecho

el paso a los vehículos de gasolina y gasoil por cuestiones medioambientales por cuestiones de salud de la población y que hay informes que llevan años ya advirtiendo de que este cambio es inevitable yo tengo aquí uno editado por una de las principales consultoras tecnológicas alemanas roland berger en dos mil dieciséis

la evolución invariablemente resulta en la extinción de las especies automovilísticas incapaces de adaptarse asegúrese usted de que es uno de los

también las que están instaladas en españa y en euskadi

que la transición se va a tener que hacer sí o sí el asunto es cómo la estamos afrontando aquí en euskadi cómo la están afrontando los gobiernos cómo tenemos aquí a un partido socialista que defiende el plan renove del gobierno vasco para comprar vehículos de gasoil cuando tiene el propio gobierno socialista de españa un plan movea exclusivamente dirigido a comprar vehículos eléctricos quién está equivocado señora corcuera el señor sánchez o la señora tapia lo sabe usted yo creo que usted lo sabe también

y sabe como yo y lo sabe también el señor tellería que ha salido esta semana

es decir la diputación de bizkaia va por un lado y el gobierno vasco y la señora tapia van por otro

la vuelve a haber y la cuestión es cómo van a reaccionar nuestras instituciones porque decir como dice el señor tellería que la industria ya se está encargando

a pilotar esta transición renunciar a pilotarla es que nos suceda

a méxico y entonces cuando esto suceda que no habremos creado ninguna ponencia no habremos hecho nada qué vamos a hacer

eso es lo que tenemos que plantearnos si empezamos por una vez a trabajar antes de que llegue el problema

trabajando cuando ya tengamos el problema encima y sea imposible quitárnoslo y salvar los empleos que ahora mismo y coincido con la señora lópez de ocariz están en
riesgo en euskadi eskerrik asko becerra jauna

sí gracias yo voy a comenzar por el final de mi intervención porque señor becerra

los socialistas digamos que consideramos el sector de la automoción en un escenario de transformación y que hay que tener en cuenta que la energía es un vector

al sector de la automoción y parece que a usted le molesta que los socialistas reconozcamos eso yo ya sé que le pone a usted nervioso que cuando hablamos de

valerianas y todo pasa y sabe por qué pasa todo porque llega un momento en el cual

que los acuerdos a los que llegamos en este parlamento cuando hacemos enmiendas transadas por unanimidad por acuerdos amplísimos si los mantuviesemos más de noventa días

pero es que no está ocurriendo eso es que lo que pasa señora larrión cuando usted habla

yo al menos no achaque a mi grupo que no vamos a participar en la ponencia yo no he dicho eso ni por asomo

que participamos de todo incluso en votaciones que no nos gustan los temas no como otros que se dedican al no voto en determinados momentos cuando no les interesa que se alcance un acuerdo y prefieren no contar y hablo de euskal herria bildu

en eso de no votar y no participar por lo tanto el grupo socialista jamás jamás ha participado siempre en todo

en este parlamento más más me entiende no señora larrión que vamos a participar con muchas ganas además mire usted porque no preferimos como decía antes el señor becerra preferimos lo que tenemos y no mover nada a nosotros nos están contando esta milonga cómo que nada se mueva y que eso es lo que quiere el gobierno

y no ha sido así ni por asomo mal que les pese a algunos no ha sido así y menos con la transición energética

por eso lecciones poquitas decía usted nunca es suficiente el trabajo efectivamente

pero que se han dado pasos por lo menos hay que reconocerlo

que los pasos que se han dado son primero de cumplimiento de los acuerdos que llevamos a cabo en esta cámara y si esos acuerdos son democráticos por lo tanto que se pongan en marcha y ustedes

la comisión de expertos para el pacto vasco de la energía no sabemos qué ocurrirá con ello

plantean ustedes para una humilde ponencia de un año oiga si todo es así

todas las ponencias que quisieran para solventar los problemas de los sectores estratégicos en el plazo de un año la verdad es que hemos debido de perder bastante el tiempo en esta cámara cuando se pueden solucionar las cosas con una ponencia en un año y me refiero también al tema de la ponencia de la margen izquierda que también trajo lo suyo

que un año yo le digo señora larrión el sistema parlamentario es verdad usted decía

de que no trabajen ustedes contra el parlamento nosotros jamás trabajaremos contra el parlamento jamás no lo hemos hecho nunca nunca pero sí

respeto a las decisiones que se toman democráticamente

no pido más y no pido menos respeto a la democracia parlamentaria por los acuerdos que hemos adoptado tanto en octubre del año dos mil dieciocho como el pasado catorce

he escuchado muy atento señora larrión su lección sobre lo que va a ocurrir con el sector de la automoción con los coches los puentes los bostg las carreteras

está muy documentada me imagino que no lo ha sacado de la wikipedia de la automoción ahora bien la pregunta es eso es lo que va a ocurrir o es lo que usted ha leído que alguno dice que va a ocurrir es que no sabemos lo que va a ocurrir no sabemos por dónde va

para empezar si la ponencia sale el primero que se va apuntar entusiasta voy a ser yo

una ponencia va a resolver las dudas que todo el mundo tenemos

porque yo lo que planteo es eso eso es básicamente lo que planteo no sabemos lo que va a ocurrir y los expertos nos van a trasladar

los representantes de los trabajadores de la mercedes en juntas generales de álava pidieron no una ponencia una mesa de negociación con empresarios y con administración

y ese es un ámbito en el que seguramente se pueden arreglar las cosas ahora ese es un elemento y luego el otro elemento aparte de que no se resuelve lo que decidamos en euskadi porque también le vuelvo a repetir

incluso excede el ámbito europeo pero trabajemos por lo menos en el ámbito europeo y aquí qué vamos hacer

le vamos a poner mucha ilusión le vamos a poner muchas ganas pero yo a pesar de que voy a trabajar con ilusión tengo muchas dudas de que resolvamos en una ponencia nada

el pacto de la energía esto entra de lleno en el pacto de la energía

nosotros nos vamos a replantear el pacto de la energía después si esto sale aprobado por qué porque por lo menos deberíamos de trabajar

no podemos estar trabajándolo en distintos ámbitos parlamentarios o extraparlamentarios no digo yo digo yo porque

y esta vez ahora voy hablar un poco de ética parlamentaria que he citado antes

de la palabra dada y de las conversaciones tenidas y señora lópez de ocariz nuestro romance tiene un bache tiene un bache no

una de estas donde ayer todavía a la tarde le preguntaba

esto no es correcto y yo me llevo un disgusto no solo porque el romance tiene un bache sino porque además voy a perder la votación y porque además

pero esto me hace pensar que los puentes que desde la izquierda están intentando volar como he dicho ahora ustedes han decidido darles las cerillas

darles las cerillas para colaborar miren nosotros vamos a seguir resistiendo vamos a seguir resistiendo vamos a ir a la ponencia vamos a estar en la ponencia vamos a aportar en la ponencia y desde luego lo que no le voy a admitir es que diga que estamos contra el parlamento mire

qué decidió juntas generales de gipuzkoa no a la incineradora qué hizo la diputación foral de gipuzkoa al revés pero qué hizo la diputación

el parlamento ir contra el parlamento y ahora le voy a decir otra cosa el otro día aprobamos crear un grupo de expertos para trabajar el pacto de la energía en el parlamento lo decidimos qué es ese grupo de expertos no es una

nosotros tener una ponencia no eso es lo mismo eso es lo mismo y les vuelvo avisar

y nos veremos tarde que temprano nosotros sujetándolos y ustedes empujando cómo
esto es todo muchas gracias eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta

eguerdi on eskerrik asko presidente andrea aclarar lo primero que esta iniciativa

nos denominara tridente opositor digo por si alguien tiene algunas dudas

debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación racial religiosa o de otra índole y los estados

el estado debería garantizar primero la aconfesionalidad y sobre todo la separación efectiva entre las instituciones y las confesiones religiosas y entre estas instituciones tenemos la escuela pública en la que se debería garantizar esa separación efectiva por dos motivos neutraltasun ideologikoa bermatzeko

ni la igualdad está garantizada en absoluto en este momento en este sistema educativo eta gehiago esango nuke kontzientzia askatasuna ez da bermatzen gure hezkuntza y por qué no se garantiza porque se permite el adoctrinamiento en el espacio público

adoctrinamiento no se debe entender en un término como un término

y enseñanza de la doctrina en este caso de la doctrina religiosa que es lo que está sucediendo en este caso en euskadi doctrina por si queda alguna duda todavía es un conjunto de ideas enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso ideológico etcétera

en este momento la enseñanza de la historia la enseñanza de los factores sociales culturales que dieron lugar a un hecho religioso no se pueden

religioso que es como decía la enseñanza de la doctrina

donde dice que los estados respetaran del niño o la niña la libertad de pensamiento

que por un lado los niños y las niñas no tienen desarrollada su autonomía en el momento en el que les imparten sus estas enseñanzas y por otro lado que además son separados y son separadas por sus creencias

religioso y esto pasa todos los días en las aulas de euskadi en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada

no entendido de forma peyorativa sino como lo que es que es la enseñanza de una doctrina y por lo tanto

superior del niño es el que debe prevalecer y de la niña tendríamos que añadir ya en este momento y además este parlamento también

insertado en todas las políticas públicas interés superior que tiene que estar por encima de concordatos de acuerdos educativos con la santa sede y también por encima de los conciertos educativos con los centros religiosos los derechos del niño y de la niña son y tienen que estar como digo por encima de todas esas consideraciones y eso no está sucediendo por eso la iniciativa que traíamos hoy aquí era muy simple y sigue siendo muy simple muy concreta y muy clara en la transacción que hemos pactado con euskal herria bildu

y por tanto plenamente laica sigue siendo una asignatura pendiente en el sistema educativo vasco sé que nos dirán que en otros países también pasa en otros países supuestamente laicos pero bueno para mí el ejemplo es francia

la escuela ha de educar sin dogmas en conocimientos científicos y universales en valores humanistas en el respeto a los derechos humanos en la asunción de la diferencia y de la diversidad sobre la base de la igualdad en dignidad y la igualdad en derechos en los principios

democráticos que son comunes a todas las personas y en consecuencia por tanto consideramos que la religión

y sus actos y símbolos deben salir del currículum y deben salir del ámbito escolar por desgracia las políticas educativas tanto en el estado con la lomce fundamentalmente como en euskadi también con

he explicado ahora lo que deja clara constancia de que disponer en este momento en euskadi de prácticamente plenas competencias en materia educativa no nos libra del diseño de políticas educativas fundamentadas en el respeto

conciencia uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos los centros escolares no pueden ser en ningún momento un lugar de exclusión

en euskadi día a día niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o las convicciones de sus familias y mucho menos por su sexo y por su género como también pasa todos los días euskadi en consecuencia la religión en sus formas confesionales vuelvo a decirlo debe salir del currículum del currículo y del ámbito escolar

se extiende al conjunto del sistema educativo vasco con independencia de su titularidad porque el derecho a

universal y nadie ningún niño ni ninguna niña en nuestro país puede ser privado derecho además en la propuesta de transacción

con eh bildu lo décimos muy claramente muy claramente que manifestamos nuestro profundo respeto al sentimiento religioso de la ciudadanía y también a los sentimientos agnósticos o a las creencias mejor dicho agnósticas y

instamos como decía a garantizar el carácter laico de la escuela e instamos al gobierno a realizar un plan en tres meses para

y además para que quede claro instamos al gobierno a que garantice también en el currículum el conocimiento sobre las diferentes religiones del mundo

la inclusión y con un punto de vista no dogmático crítico y científico y además este tema de la confesionalidad y de

en la educación en nuestro país para muestra la huelga de la concertada y para muestra el problema que tenemos con los profesores de la religión y para muestra tenemos

de la religión católica del conjunto del resto de profesores de otras ramas creo que para muestra varios botones las administraciones públicas han de garantizar el derecho universal a la educación vuelvo a decirlo en términos de igualdad

al derecho igualmente universal a la libertad de conciencia y a su formación en el marco escolar

todo ello además en un proyecto de sociedad en un proyecto común para la ciudadanía inclusivo y no segregador y además creo

debería ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad que solo se puede vivir libremente eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

bueno señor martínez la verdad para ser una proposición muy simple pocas veces he visto una justificación tan larga en el cuadernillo es decir sí la proposición son cinco líneas pero ha necesitado usted justificarla con párrafos y párrafos

pero quiero decirle que de simplicidad nada luego hay otra cosa breve que me gustaría decirle vamos a ver ustedes

han tenido la posibilidad de cambiar todos los artículos en la legislación sobre esta materia que nos obligan es muy fácil traerlo aquí a este parlamento pero por qué no lo han hecho ustedes en las cortes generales podían haberlo cambiado tenían los apoyos suficiente ah pero no

preferimos traerlo aquí bueno voy a empezar por

de dónde estamos porque es que a veces tengo la impresión de que ustedes viven en una burbuja y nos describen como si ya fuéramos lo que ustedes legítimamente quieren que seamos

eso no es cierto ustedes enuncian en presente cosas que tenían que anunciarlas en potencial y enunciándolas en potencial estarían legitimados

vamos a ver empecemos por la declaración

el artículo veintiséis dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana

veintiséis y en el punto dos establece el derecho de los padres el tipo de educación estamos hablando de la declaración de derechos humanos vamos un poquito más concreto vamos a ir a nuestra propia constitución en el artículo dieciséis punto tres ninguna confesión

los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones en su interpretación el tribunal constitucional ha definido el país a raíz de este artículo como un estado

inmediatamente después de decir esto la constitución dice que en el veintisiete punto tres el que he leído antes era el dieciséis pero en el veintisiete punto tres dice

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones porque usted habla de la libertad cómo ha dicho la libertad de conciencia de una criatura

yo creo que tendrán que ser sus padres que por cierto han optado por no elegir la asignatura libremente pero han optado ellos porque con tres años

de conciencia poca se va a poder ejercer y así le hablo figúrese el tope que ponen ahora los psicólogos es a partir de los veintiuno y veintidós años

cuándo dicen los científicos que se está plenamente maduro para ejercer todos esos derechos a partir de la maduración

bueno hay una cosa que ha dicho usted que me ha encantado que le voy a decir y es cierto le voy a decir todos los países que tienen otra situación distinta a la que usted desearía

bueno usted sabe que francia en dos mil dos

que era socialista como usted sabe muy preocupado por carencias que estaban viendo en la educación pidió un informe sobre si debiera introducir el hecho religioso en la educación

y en dos mil seis la asamblea nacional aprobó introducir el estudio del hecho religioso

pero no la contravino eh y a raíz de lo cual hay departamentos en francia que han introducido el hecho religioso en sus curriculums en una parte muy pequeñita porque son muy centralistas

y lo han introducido así es que señor martínez qué pena hasta francia le ha fallado

y bueno ahora sí que me va a permitir que haga un repaso por lo que pasa

como suecia que nadie llamará retrógrado como finlandia o como grecia

el estudio de la religión es obligatorio es obligatorio algunos incluso lo tienen metido en sus constituciones sus constituciones establecen que se deberá estudiar religión eso a mí la verdad ya me parece que es ir demasiado lejos

en la declaración de derechos humanos que dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y consideran que sin el estudio del hecho religioso la personalidad humana tiene más dificultades de desarrollo

vamos a ver bueno lo de francia ya se lo he contado puedo contarles suecia croacia

entonces vamos a ver yo creo que aquí tenemos un choque entre lo que es su burbuja en la que pretendemos que todos somos como a ustedes les gustaría y la realidad

y además le voy a decir algo que me llama poderosamente la atención creo que ustedes

es un valor positivo pero ustedes hacen una incidencia en ella tremenda

es a una uniformidad total ustedes desean o parecen desear por lo que dicen una sociedad en la que nadie estudie religión

profesemos la ideología de género en la que todos asumamos

y entonces cuando seamos todos uniformes uniformes uniformes ustedes hablarán de diversidad

la diversidad es que podamos convivir gente que estudia y practica religión

gente que cree firmemente en la ideología de género

que echa de menos mujeres sobre todo poder trabajar en casa también tienen derecho

y gente que tiene otras que tiene unos orígenes y que tiene otros

verdaderamente diversas que son muy complicadas de gestionar muy complicadas

no lo que ustedes dicen democracia igual a uniformidad nadie estudia religión todos somos laicos todos hablamos en euskera se me había olvidado todos estudiamos en el modelo quinientos de euskera

y luego seremos diversos pues no sé en qué vamos a ser diversos

en que figúrese hasta que la diferencia

yo he visto iniciativas de su ámbito cultural en las que dice que en el

qué uniformidad o no nos olvidemos del progenitor a

padres y madres es que ustedes de verdad están diseñando una sociedad uniformada una cosa les voy a reconocer que

sociedad así es fácil de gestionar pero sabe cómo se llaman esas sociedades no democráticas se llaman sociedades totalitarias la democracia precisamente es asumir todas las diversidades hombre mujer

euskera y abrir un paraguas de legislación que proteja todas esas diversidades y que solamente tenga como límite
la ley y por supuesto los derechos humanos eso es lo que nosotros queremos muchas gracias eskerrik asko de bengoechea

bien buenos días yo voy a empezar por darle la razón al señor martínez cuando decía que esta propuesta la presentó en la cámara elkarrekin podemos antes de aquellas declaraciones de ortuzar
pero mucho antes estamos hablando de una proposición que lleva doce meses durmiendo el sueño de los justos

ni importante ni transcendente para la vida de los vascos hasta justo treinta días antes de una convocatoria electoral

da la impresión de que tiene un cierto tufillo electoral después alguna precisión que yo si quería hacer porque aquí se mezclan cosas

un adoctrinamiento en el espacio público ya pero es que ocurre que aquí tenemos un sistema educativo en este país del que todos nos dotamos cuando se aprobó la ley de escuela pública vasca

que es excepcional en el conjunto europeo pero que es el nuestro es el que nosotros aprobamos en su día y que establece pues

entre otras que gran parte de los centros concertados son de confesión católica imparten la enseñanza de la religión nuestra primera obligación cuál es defender que ese adoctrinamiento no exista en el ámbito de la escuela pública que es lo que corresponde

otros podéis tener otro criterio más extensivo a mí lo que me preocupa de verdad es la escuela pública y cómo se hace la enseñanza y la educación en ese espacio me parece que es lo troncal y evidentemente sinceramente siendo muy importante el tema de la enseñanza de la religión

de lo más grave que nos está pasando o lo más preocupante dentro del sistema educativo vasco pero voy a empezar por marcar un poco la posición de los socialistas respecto a este asunto y no creo que quepa ninguna duda que para nosotros para los socialistas la educación ha sido y es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad

innata en el adn del partido socialista y además consideramos que es una de las piezas esenciales para promover la igualdad de oportunidades y para la construcción de una convivencia democrática

solidaridad que sea responsable e inclusiva y por ello reconocemos y queremos hacer especial hincapié en el papel de la escuela pública vasca y en su carácter laico promovemos un modelo de educación integral adecuado a la nueva ciudadanía del siglo veintiuno en el que se le dote al alumnado de una visión crítica

de herramientas útiles que les ayuden a discernir por ellos mismos y a generar su propia opinión crítica y apostamos no nos cansaremos de repetirlo por una escuela pública laica

y que defienda la ética pública y los valores democráticos y siempre hemos defendido la asignatura de educación para la ciudadanía ahora denominada de valores éticos y cívicos lo pusimos ya en marcha con el gobierno de josé luis rodríguez zapatero y siempre ha sido defendida aquí y ahora en el congreso

y por todos los socialistas el hecho de que la educación sea laica no va implícito necesariamente que sea contraria a ciertos valores religiosos creo que en eso coincidimos todos o que defienda una postura agnóstica

busca la reflexión humana basada en la libertad de pertenencia pensamiento o creencias y por eso el sistema educativo tiene que velar por los intereses de los alumnos y alumnas y debe regirse

y los centros escolares no pueden ser motivo ni lugar de exclusión ni de discriminación y tampoco de segregación sino de inclusión diversidad e integración porque nos tenemos que dar cuenta que este mundo avanza y con él la sociedad

y el sistema educativo tiene que dar respuesta a todas estas realidades

a que aprendan hacerse y realizarse es necesario educarles en valores

y universal los valores cívicos han de serlo así universales y por tanto todos los alumnos y alumnas han de cursarlos las religiones no deben tener valor académico

por ello no puede existir una asignatura que sea alternativa la asignatura de los valores éticos puesto como he dicho estos valores al ser universales ha de ser cursada

para que sean libres y para que sean ciudadanos con criterio propio para promover una sociedad plural inclusiva justa tolerante y democrática

no estamos discutiendo aquí sobre el hecho religioso el problema es que se suele tender a confundir la información o la discusión o el debate sobre el hecho religioso con la aceptación de la religión católica porque lo que se enseña en los colegios concertados en su mayoría de confesión católica no es el hecho religioso se enseña la religión católica

otros hechos religiosos distintos protestantes metodistas musulmanes

pero eso no se enseña en los centros religiosos se enseña la religión católica

la enseñanza de la religión católica con el hecho religioso que es muchísimo más amplio pero en todo caso nuestro deber es trabajar para garantizar la educación

y que avance en un contexto de transformación con la actual globalización la complejidad de esta sociedad y la fragmentación social y por eso queremos hacer una apuesta inequívoca por la educación inclusiva por la cohesión social y por la gestión de esa diversidad por eso hemos presentado una enmienda en conjunto con el grupo parlamentario nacionalistas vascos que viene a decir el parlamento vasco reconoce el papel esencial de la escuela pública vasca y su carácter laico he insta al gobierno vasco y al departamento de educación

las necesidades específicas y la autonomía del sistema educativo y a que garantice un sistema educativo público de calidad en condiciones de igualdad y de equidad

la otra parte del sistema educativo que son los centros concertados

enseñanza de la religión católica es cierto pero ese es el sistema que nos dotamos y que aprobamos y yo estoy dispuesto a aceptar la discusión de que podemos cambiar ese modelo y hacerlo más

la escuela privada o es residual como puede ser en francia pero hoy tenemos el marco legal que tenemos y si queremos otro peleémoslo por sacarlo pero entonces dígase también aquí nosotros tenemos la capacidad de plantearlo en lo que nos corresponde como administración pública en la escuela pública

que es lo más que podemos hacer lo que nos corresponde con aquellos otros centros es verdad que sostenidos con fondos públicos
otra forma de ver la vida y a lo que los padres por cierto van o deciden ir libremente eskerrik asko pastor jauna

el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones horrela azken eskubide hau nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología religión o creencia oinarrizko eskubide bezala ezartzen duen

todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes han de ser en efecto neutrales

en general y específicamente un estado que se declara aconfesional el de rechazar cualquier actitud religiosa del estado en relación con la persona

la obligación de los poderes públicos de no imponer coercitivamente el estudio de una concesión ideológica o religiosa determinada eta aurrerago el artículo veintisiete punto tres de la constitución garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral

el derecho a la neutralidad ideológica de los centros docentes públicos tal como declara la citada sentencia de este tribunal de trece de febrero de mil novecientos ochenta y uno

al hilo de la libertad de conciencia señor pastor decían que

los que tenían la conciencia tranquila y creo que durante este año si he podido dormir tranquilo sin presentar esta iniciativa es precisamente

presentar esta iniciativa que no hemos presentado como carácter de urgente ni es la primera vez que presentamos iniciativas

me dice que lo presente en el congreso se aprobó en esta legislatura una propuesta no de ley

del partido socialista que curiosamente aquí no respalda iniciativas similares y en cuanto a burbujas las únicas en mi caso las de juan luis guerra todas las demás burbujas

de derechos humanos en la declaración de los derechos de la infancia

ha dicho a transformarla igual que el estatuto de autonomía del país vasco igual que la ley de educación

tan radical que defiende la igualdad entre hombres y mujeres creo que bueno si hay alguien que está en contra de la ideología de género que usted dice pues bueno su conciencia o su estado con su conciencia pues cada uno se lo mira y uniformidad señora de bengoechea uniformidad

es no reconocer la laicidad del estado la laicidad defiende la pluralidad de ideologías y la pluralidad de religiones y la neutralidad del

a los géneros o a las personas no binarias por ejemplo o aceptar que haya niños y niñas que vayan a colegios

separados o colegios segregados y eso va también por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi

en euskadi y uniformidad precisamente también es tener acuerdos privilegiados el concordato y los acuerdos educativos

con el estado vaticano eso es por ejemplo lo que es uniformidad

hablaba de que quizá se haya aprobado habría que entrar en detalle eso que usted ha dicho y asumiendo que es cierto

de diplomacia pública del estado de francia la separación entre las iglesias y el estado significa que la república francesa no reconoce no paga salarios ni subvenciona ningún culto el estado no tiene ninguna confesión religiosa las iglesias se administran libremente y

de eso estamos lejos de eso estamos lejos y vuelvo a decir la señora ubera también

laiko bat bermatu behar duena y luego me ha hecho mucha gracia la enmienda que presentaba el grupo parlamentario nacionalistas y socialistas vascos

es el carácter laico de la escuela pública si se enseña enseñanza religiosa como ha dicho el señor pastor de religión

y profesoras designados por la iglesia católica eso es una educación laica yo creo que no

hay un debate con la prohibición de los toros hay muchos que dicen que van a morir

tranquilamente porque cada vez va menos gente puede ser que la educación pública lo mismo que las plazas de toros va cada vez menos gente

a sus hijos y a sus hijas en la enseñanza religiosa puede ser que ese sea

de oro en la siguiente legislatura en el congreso y también a través del debate de la ley de educación vasca que supuestamente el gobierno va a traer para garantizar la laicidad del sistema educativo vasco y señor pastor usted está en el gobierno

y se acabe con una enseñanza privilegiada una religión que no estamos hablando de acabar con la enseñanza del hecho religioso y de la historia de religiones en esa asignatura por ejemplo o de otra manera no estamos hablando de eso estamos hablando de acabar con la

parece aquí estamos en un problema denominalismo porque resulta

martínez como por mí dan pie a decir cosas distintas el partido nacionalista vasco defiende el carácter laico de la pública el señor pastor parece que por laico entiende una cosa que no es la normalmente yo creo que aquí estamos en unos debates nominalistas totalmente y bueno usted como gran victoria me dice que ha presentado una pnl en su grupo en el congreso que ha sido aprobada

necesitarían ustedes una propuesta de reforma constitucional que como esto no reformada

podrían haberlo sacado y no lo han presentado y tenían mayoría suficiente

y no lo han hecho se me ocurre una frase tan machista pero tan histórica

no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre es que es machista

aquello que no ha sabido usted defender en madrid y ya les digo me encanta escandalizar si encuentro un poco más machista también la digo pero es machista

bueno vamos a ver señora ubera me ha venido muy bien una cosa que ha dicho usted y es que ha llevado el debate lo ha sacado

señor martínez ha visto usted que en eso que nos ha leído de francia no se menciona explícitamente la educación y eso es por la aprobación en la asamblea de dos mil seis

de la educación nos lo ha leído usted literal señora ubera mire usted ha llevado el debate al ámbito público eremu publikora

porque mire si la religión y una en particular va a estar presente en el espacio público en fechas próximas tenemos procesiones en balmaseda hondarribia lagrán

berango durango bilbao segura vitoria uff eso es eremu publikoa y es eremu publikoa

y lleno de gente que les encanta o sea que comprendo que ustedes las quieran sacar pero la verdad yo me siento bastante respaldad por la ciudadanía cuando digo que pues que salgan

pero ya ve usted que el eremu publikoa ez da bakarrik eskolak kaleetan baizik ere y van a estar llenas llenas los de hondarribia por favor déjemelos que son muy graciosos van vestidos de romanos y eso me chifla entonces vamos a ver y el señor pastor

porque nos gustaría porque nosotros querríamos porque no sé qué pero señor pastor

si han tenido mayoría suficientes y tanto la logse como

como los decretos no han cambiado no han cambiado nada lo han dejado como está acuérdese de boabdi el chico entonces

de adoctrinamiento bueno yo no sé a qué colegios han ido ustedes

se estudia el hecho religioso fundamentalmente

puede entrar a vigilar el currículum puede entrar perfectamente y por último tenía algo que decirles también pero en fin yo creo que eso es suficiente el hecho religioso es un hecho

por todos los derechos internacionales el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos también y si no lo quieren pues hagan alguna revolución pero

en el congreso de los diputados y además le voy a decir una cosa podía haber muchos temas en los que podríamos coincidir

mire vivan vivan porque nosotros les vamos a apoyar para que ustedes vivan pero por favor dejen vivir gracias eskerrik asko de bengoechea

señora bengoechea viva y disfruta de la vida lehengo haritik azpimarratu nahi dut diru publikoaren erabilera

bien vamos a ver si precisamos algunas cosas ha salido el tema de los profesores de religión

de resto atávico que queda ahí desde el principio cuando durante un tiempo se establecía la enseñanza de la religión católica

desde luego nosotros vamos a defender y así lo hicimos en la comisión su puesto de trabajo

pues tendrán que dar otro tipo de asignaturas pero creo que es un colectivo de trabajadores que son perfectamente respetable

y nosotros estamos haciendo la defensa de la escuela pública vasca en cuanto entendemos que es la escuela pública la que tiene que mantener ese carácter laico

porque cambió la normativa estatal como usted sabe perfectamente

dentro del currículum educativo algo que por cierto señora bengoechea ya se ha retirado por un gobierno socialista que algo ha hecho en este tiempo y seguiremos haciendo más y seguiremos haciendo más aunque a ustedes y al señor rivera no les guste esta historia

en ese sentido porque pensamos que es el futuro de la educación parte de eso de una escuela que sea neutral ideológicamente que hable del hecho religioso por supuesto cómo no vamos a hablar del hecho religioso en europa que es parte de nuestra historia

lo es también las otras confesiones religiosas de europa y de fuera de europa y eso es algo muy distinto a la discusión que plantean algunos defensores a ultranza

católica y entonces sí que estamos estableciendo una división insoportable entre

y se saltan un criterio de neutralidad ideológica que debe de mantener siempre el estado y eso hay que cuidarlo también en este caso en la escuela pública y también en la escuela

fondos públicos luego yo les decía aquí tenemos un modelo especial que se dio en euskadi por determinadas circunstancias entre otras cosas porque aquí teníamos una red

una auténtica anomalía en el resto de españa y en el resto de europa lo es lo es a mí me gustaría otro modelo distinto y supongo que a algunos de los

que tenga que traer el gobierno se plantea ese debate nosotros estamos dispuestos perfectamente a entrar en ese debate en respecto a qué papel tiene que cubrir la enseñanza

con qué recursos y con qué sistema entremos de verdad en eso

horrelako eztabaida bat porque entre los municipios del cambio había un tal señor kichi que le había dado la medalla de oro de la ciudad a la virgen del rosario

sí señor y justo seguido de eso entra esta iniciativa que se acaba retirando el veintitrés de marzo

el día que casualmente un grupo llamado europa laica interponía una demanda contra esa decisión

un año el sueño de los justos y ahora pues al parecer toca toca hablar de esto vaya usted a saber por qué cálculos

con una cosa yo creo que el concepto

religiosa de conciencia de culto debe de estar por encima de todas las cosas y creo creo sencillamente que

nunca se ha garantizado ni se garantizará mediante la uniformidad